a los dignos representantes de la asociación por el derecho a una muerte digna

que tienen un proceso de militancia resistencia civil envidiable

que no por ser delicado no entronca directamente con la cultura de los derechos civiles no estamos hablando de otra cosa a treinta años del suicidio de

hasta más de dieciséis ocasiones el parlamento español no ha tenido en cuenta ni siquiera el debate del derecho a la ley de eutanasia

desde el dos mil dos que se aprobó la ley de autonomía del paciente se ha creado un marco jurídico suficiente para poder discutir libremente de estos temas elkarrekin podemos apoya sin duda la importancia iniciativa de la compañera

iniciativa legislativa que está en la ley para que este parlamento vasco proponga a las cortes generales la modificación del artículo

del código penal cualquier médico que en este momento o cualquier persona intervenga en un proceso de eutanasia o

se somete a dos o diez años de cárcel

no se puede gestionar de forma tan equivocada el dolor de la gente

en este país gestionando inadecuadamente el dolor de muchas familias

sino de otras muchas familias anónimas que no puede tomar decisiones al final de su vida

no solamente el parlamento de cataluña ya en dos ocasiones ha hecho esta propuesta legislativa ya hay otra propuesta legislativa del psoe que por el sesenta por ciento de los votos del parlamento doscientos ocho exactamente el pasado veinte de julio de dos mil dieciocho aprobó el debate

suicidio asistido en nuestra opinión es un tema que no se debe burocratizar hay gente que lo está pasando mal como decía bien

no es un tema médico pero por si a alguien le interesa el único colegio de médicos del estado español que ha hecho una encuesta entre sus colegiados que es el de bizkaia hemos estado de acuerdo

hay más encuestas hay más investigaciones pero por si a alguien le interesa el problema médico

algunos asuntos y animo a los partidos políticos que estamos en este parlamento para

se pueda corregir algunas dificultades que la propuesta del partido socialista actualmente en debate pueda llegar a su fin de forma satisfactoria

se legisle en burocratizar el acceso a dichos derechos en nuestra opinión el primer asunto de la ley que

bildu como el psoe como elkarrekin podemos discutamos en el parlamento español próximamente si se conforma el parlamento español

generales otra vez claro estoy hablando de un escenario político de estabilidad el primer asunto que nos preocupa es la excesiva burocratización supuestamente garantista del ejercicio del derecho

el paciente o la persona que ejerce el derecho o sus familiares necesiten un médico consultor luego otro médico consultor y luego

para dar el visto bueno al ejercicio del derecho nos parece excesivamente burocrático

no existe parangón de este proceso en la toma de decisiones

no menos preocupante que haya diferencias territoriales en las comunidades autónomas para el visto bueno del ejercicio de este derecho imagínense ustedes por ejemplo imaginaos

autónoma para garantizar para dar el visto bueno a este derecho de cualquier familia de cualquier persona formada por el pp y por vox

lógicamente o dilatan en el tiempo o frenan el ejercicio de este derecho aumentando el dolor de las familias que así lo deciden imagínense que en otra comunidad autónoma forman comisiones

a este tipo de derechos formada por formaciones políticas que están de acuerdo los tiempos la agilidad y la permisividad sería mayor esto puede crear procesos de migración entre comunidades autónomas a parte de desigualdades más que obvias este es el segundo aspecto que animo

del debate de la ley que esperemos sea próximo otro aspecto que nos parece interesante

es la oportunidad de que haya supuestos para tomar decisiones

de un proceso irreversible de cercanía de muerte dos asuntos que no se han contemplado en la ley dos supuestos que no se han contemplado en la ley que otros países

uno es el tema de los menores para acceder a este derecho y otro es el tema de los enfermos mentales graves

la ley no lo contempla es un tema delicado es un tema complejo bajo el punto de vista de los derechos bajo el punto de vista de su ejercicio y de la decisión del final de la vida pero

es un tema que se da en la sociedad actual sociedad madura sociedad que tiene ya cierto nivel de consenso con el asunto nuestra sociedad no es menor de edad tiene ya criterios y por lo tanto estas tres cuestiones nos parece que

para la aprobación de una próxima ley de eutanasia

repito los tres primero excesiva burocratización para el ejercicio del derecho segundo la supuesta

comunidades autónomas para dar el visto bueno al ejercicio del derecho

algunos supuestos de algunas personas de algunos ciudadanos o ciudadanas como los menores de edad y los enfermos mentales graves que no se contemplan en la ley que está discutiéndose no se puede confundir la compasión con el derecho aquí estamos hablando de derechos civiles no estamos hablando de calidad cristiana no estamos hablando de compasión no estamos hablando de

estamos hablando del ejercicio pleno de personas autónomas recuerdo que la ley autonomía

dos mil dos la autonomía y la autoconciencia acompaña a las personas hasta el final de su vida por lo tanto una vida digna necesita

es una opción libre quien no la quiera tomar que no la tome

burocráticos ni legales ni sujetos a represión de ningún tipo insisto que elkarrekin podemos saluda esta iniciativa

con su personalidad jurídica puede junto con el parlamento de cataluña y junto con la ley que está ya en la mesa pueden hacer que el debate sea rápido que se acabe el sufrimiento de muchas familias que el debate sea bueno que sea profundo y que tenga

poca cortedad de miras que sea amplio bajo el punto de vista

no sean difíciles de acceder a ellos no tengo más que decir en principio nos gustaría que este asunto que ya se ha demorado bastante

en el marco de euskadi próximamente saludamos y apoyamos esta iniciativa eskerrik asko eskerrik asko uria jauna aurkako txandarik ez dago beraz

presidenta lehendakari consejero consejera señorías buenos días a todos y a todas bien opuesto a la toma en consideración de esta proposición de ley a tramitar como iniciativa legislativa ante las cortes generales por una cuestión de fondo

por cuestiones de forma en lo relativo

de lo pretendido mi grupo hace un planteamiento el que hemos hecho el que

ayudar a vivir como prioridad y que nuestros esfuerzos y los esfuerzos de la sociedad y lo esfuerzos de los poderes públicos

los trabajos de la sanidad de los servicios sociales de la sociedad sean ayudar a vivir dar valor a la vida siempre esa es nuestra prioridad y es el planteamiento de inicio que hacemos en relación con esta cuestión desde luego

la dignidad de las personas en el proceso final de la vida

que hemos aprobado en este parlamento vasco y para ello el sistema público además cada día se ha ido dotando de mejores medios posibilidades en esa transición de las personas

personas profesionales tratan de garantizarlo todos los días esa dignidad en el proceso final de la vida lo tenemos comprobado cada día

no compartimos por otro lado ese planteamiento de eutanasia y menos a través de una proposición de ley

planteada y fundamentada como esta para fundamentar debates como este tiene que haber un trabajo muy riguroso que esta iniciativa no tiene y además

que tienen los proponentes de esta iniciativa hemos votado en contra porque entendemos que es una iniciativa pésima es una iniciativa oportunista incorrectamente redactada una técnica legislativa lamentable y con una pretensión política que no compartimos esta iniciativa es una chapuza legislativa que no se podía admitir a consideración desde luego en ningún caso ya

en la admisión a trámite de esta iniciativa o de este tipo de iniciativas que no se fundamentan solo en un artículo o en una petición de modificación sino en muchas peticiones que son un trámite distinto a una proposición de ley pero en cualquier caso ahí está y ese debate lo tenemos aquí y hemos tenido la oportunidad de

además los proponentes han tenido y tienen

un camino para impulsar reformas legislativas del código penal o planteamiento e impulso de nuevas leyes a través de su grupo en las cortes generales habrán tenido ocasión de hacerlo lo podrán seguir haciendo y no este totum revolutum que en cuatro páginas de una mala iniciativa quiere despachar una cuestión de tanto calado ético de tanto calado jurídico como esta

se ve una muy deficiente redacción que más parece una proposición no de ley normal ordinaria de esas que debatimos tan a menudo que un precepto legal se articula en las disposiciones un sinsentido de instancias al gobierno de españa que no están fundamentadas que no están justificadas y que además están mal planteadas alguien hablaba en la tribuna antes de que es un tema complejo y delicado lo ha dicho uno de los intervinientes en el turno a favor pues es todo lo contrario lo que hace esta iniciativa un tema tan complejo y delicado lo trata con una frivolidad desde luego

es patética el ver y comprobar cómo alguien puede tratar un tema tan complejo tan delicado con tanto

filosófico biológico de esta manera debates que hoy se desarrollan además por la doctrina por la universidad por la academia

hoy con un alto grado de frivolidad los proponentes trataban de plantearlo como si fuese una simple cuestión de menor calado una cuestión competencial una cuestión de competencias administrativas cuestiones como estas no se plantean así y lógicamente vuelvo a decir por una razón de fondo la primera que he explicado y por una cuestión de forma

mi grupo señora presidenta termino tiene una posición de defensa de la vida en este y en otros muchos aspectos y muchos asuntos y también

y de seriedad en los planteamientos políticos que se proponen a esta cámara muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak castelo

la presente ley pretende dar una respuesta jurídica sistemática equilibrada garantista a una demanda sostenida de la sociedad actual como es la eutanasia podría ser el inicio de la iniciativa presentada para este parlamento pero no no lo es lo que les estoy leyendo

en el congreso de los diputados por el grupo socialista y que fue tomada en consideración en el hemiciclo el veintiséis de junio del dos mil dieciocho con los votos a favor del grupo socialista

y del grupo mixto entre este grupo mixto estaban los votos de eh bildu doscientos ocho votos a favor de regular

noes por tanto en el congreso de los diputados y a instancias del grupo socialista ya se va a debatir una ley que contempla entre sus disposiciones

ese ha sido el motivo fundamental para que nuestro voto haya sido negativo a la toma en consideración de esta iniciativa ante cortes generales es un no a la forma pero

es un no al fondo consideramos innecesaria la iniciativa de primeras porque también sería una fórmula más lenta

congreso de los diputados lo ha dicho el interviniente de podemos ya hay una propuesta actualmente en debate y ahí en el congreso de los diputados necesitaremos llegar

porque compartimos los socialistas que desde hace ya tiempo estamos asistiendo a un amplio debate social y político sobre los derechos y garantías de todas las personas a una asistencia sanitaria y social

un debate al que se le ha unido otro sobre el derecho de las personas que sin estar

deciden por su situación de invalidez o de sufrimiento solicitar la ayuda para morir anticipadamente

lo que todo el mundo conocemos como la regulación de la eutanasia los socialistas consideramos que desde hace tiempo hay una voluntad social política y un respaldo constitucional y jurídico

este derecho porque así lo consideramos nosotros un derecho un derecho más que amplía los derechos de la ciudadanía y así lo reflejamos también nosotros en el programa electoral y en cumplimiento de ese programa electoral presentamos

ante el órgano que es competente que es el congreso de los diputados con la intención de responder de una forma serena compartida y seria a la demanda social que nos hacen los ciudadanos para la regulación legal de la eutanasia es una regulación y lo sabe usted señora ubera que va mucho más allá

porque la cuestión fundamental en esta regulación está en dotarla de las garantías suficientes la regulación que se apruebe finalmente en el congreso de los diputados

debe de asegurar que la decisión de la persona que solicita la eutanasia sea autónoma

a circunstancias que tuvieran más que ver con una falta de condiciones dignas medicas sociales o familiares para poder afrontar esa situación los socialistas y lo saben hemos trabajado

y presentar ante el congreso de los diputados una proposición de ley orgánica para propiciar una nueva conquista de los derechos y libertades civiles

se haga desde la seriedad y desde el rigor técnico que debe de tener una regulación

los socialistas hemos optado por una regulación sistemática ordenada y garantista de los supuestos en los que cabe la eutanasia sin dar lugar a reproche penal con la suficientes garantías son veintidós artículos cinco disposiciones adicionales tres disipaciones finales mucho más de lo que se ha propuesto hoy aquí

en esa proposición que está presentada ante el congreso de los diputados es por ello

es simplemente un tema de efectividad de debate con una norma o con unos presupuestos muchísimo más trabajados que los que hoy se traían aquí

señora ubera los socialistas hemos recibido los votos de su grupo en la toma en consideración nosotros lo que de verdad esperamos es que después de su tramitación también podamos recibir de eh bildu para la aprobación definitiva de la ley en el congreso de los diputados y así hacer lo que usted también ha dicho aquí que es poder regular por fin

que tengan un buen debate un debate sereno un debate profundo y que finalice con una mejor ley que amplíe los derechos de las y los ciudadanos para poder decidir sobre su vida

apuesta por la despenalización sin ningún tipo de regulación previa tan solo propone la despenalización del tipo recogido en el citado artículo ciento cuarenta y tres punto cuatro

estos también describen tipos e imponen penas haciendo referencia directa tanto a la inducción al suicidio como a la cooperación como actos

entendemos que debería darse por un lado de la despenalización pero siempre previamente acompañado de supuestos reguladores con requisitos concretos y garantías la doctrina del tribunal europeo de derechos humanos en su sentencia del catorce de mayo del dos mil trece

no tenga elaborado y promulgado un régimen legal por ello entendemos tal y como ya veníamos diciendo desde el partido nacionalista vasco que se deben abordar cuestiones que deberían acompañar a la despenalización y conformar un marco jurídico que ofrezca las debidas garantías jurídicas y condiciones para el ejercicio del derecho

forma aldetik desegokia ikusi baitugu gure taldearentzat garrantzitsuak diren eremuak kanpoan utziz estoy segura que es un deseo de todos y todas los aquí presentes encontrar la mejor solución a esta cuestión tan trascendental

el sufrimiento que conlleva para una misma y para quienes te rodean el querer morir por no poder vivir y no poder hacerlo egun hauetan olerki bat

donde yo caiga para que me abrace el sol y el viento y la luna

y luego hablaré de eso pero sí que es cierto que a pesar de que a nosotros nos parece y nos ha parecido siempre que este juicio no se hubiera de haber celebrado

no hace más que profundizar en una herida política que existe en cataluña y que ha de

y no creemos que eso deba ser algo que deba aprobar un parlamento a pesar repito de que para elkarrekin podemos como formación política

político y por último efectivamente es legítimo el desarrollo de todos los proyectos políticos por vías democráticas y pacíficas

lo que han de respetarse en nuestra opinión son los derechos de cualquier ciudadano o ciudadana que tiene a defender un proyecto político de cualquier ciudadano o ciudadana que tiene a de manera colectiva

a demandar una actualización de la estructura territorial del estado de solucionar conflictos políticos en clave territorial que es de lo que hablamos hoy aquí y que es

que elkarrekin podemos tiene que trabajar y lo que venimos trabajando

y lo que entendemos que habría que exigirle al gobierno de españa en este caso que fuera valiente

de abrir el proceso necesario para actualizar la estructura territorial del estado a una realidad plurinacional que nosotros admitimos que nosotros entendemos y que más que nunca se ha demostrado que tiene que estar reflejada en cómo se articulan los territorios en el estado

se trata de ponerle un poco de sensatez

ver qué están diciendo agentes independientes sobre esta cuestión también y bueno pues si de lo que hoy se trataba es de mostrar una posición clara

al respecto de la celebración de este juicio al respecto de la errónea celebración de este juicio

unas personas que no deberían de estarlo por haber ejercido sus derechos políticos nosotros creemos que nuestra enmienda es perfectamente válida

que la votéis porque redundaría y repetiría una posición que ya hace creo que fue en febrero de este mismo año

del juicio en estas enmiendas nosotros siempre hacemos referencia a organizaciones internacionales de derechos humanos como amnistía internacional

naciones unidas como el alto comisionado zuk ere egin dituzu

honetan y desde luego si lo que estamos hablando es también de estas personas privadas de libertad no podemos obviar hoy desde la discrepancia política

con sus opiniones en muchas de las cuestiones la situación de agravio democrático de las personas presas por esta causa no lo dudamos su encarcelamiento nunca debió de producirse sufren

judicial kafkiano con acusaciones desproporcionadas exageradas

y desde luego además que no es solo la opinión de elkarrekin podemos sino que es la opinión de amnistía internacional

no soluciona nada y no puede ser el eje sobre el que afrontar el desafío catalán

dificultará aún más la solución del conflicto es un error continuar con esta estrategia de judicialización

al desprestigio de la justicia y a la degradación de la política

la prisión preventiva de los líderes del procés es excesiva y no por una ocurrencia nuestra

así lo afirman organizaciones independientes de derechos humanos y lo mismo ocurre

del delito de rebelión o graves faltas de garantías que se dieron en la instrucción

muchas gracias señora presidenta señor lehendakari señores consejeros buenos días a todos señorías

ni en esta ni en anteriores legislaturas a hablarnos de presos políticos en un estado democrático

en esta ocasión se está refiriendo usted a una serie de personas que están siendo procesadas en el tribunal supremo no en la audiencia nacional como se dice por ahí en alguna enmienda

por la comisión de una serie de hechos que

pendientes de una sentencia usted a estas personas hoy viene aquí y nos dice les denomina presos políticos anteriormente lo ha hecho ya con otros grupos de personas usted y el grupo al que usted representa del que actúa como portavoz y nos ha llamado presos políticos a asesinos execrables a gente

que ha padecido que han cometido los crímenes más horrorosos que han extorsionado y que han destrozado la vida de cientos de miles de personas y esos angelitos

de prisión proporcionales a la barbaridad de los hechos que habían cometido eran para ustedes presos políticos entonces cuando hoy usted llama presos políticos a una serie de señores y anteriormente llamaba a los otros a mí sinceramente me produce

sea un argumento muy válido el que hable de unos y otros tildándoles de la misma forma como presos políticos pero esto

en contra de la moción que nos ha traído usted hoy aquí por eso voy a intentar profundizar más en esa idea yo parto de la base que un sistema o un país un lugar

no es un lugar democrático es decir es un país donde no existe plenamente la democracia y como yo sí que pienso

no entiendo la presencia de presos políticos como dice usted

de la misma manera que yo ha sido elegido en las urnas en un proceso y democrático elegido por los ciudadanos dentro de un ordenamiento jurídico que nos ha traído aquí y nos permite ejercer esos derechos que nos han

y una labor de control al gobierno y usted en este estado democrático en el que vive sube aquí y dice que la democracia no existe y que hay presos

y usted dice que se está juzgando ideas que se están juzgando ideologías que se están juzgando proyectos políticos incluso no estoy seguro

en este proceso jurídico y usted sabe que todo eso es mentira usted no es quién para subir aquí decirnos que este preso es político

y este tiene que estar y muchos más años en la cárcel que lo que le han caído porque esas no son nuestras atribuciones como miembros de un organismo legislativo entiendo que elegidos de forma democrática y que ejercemos nuestros derechos dentro de un ordenamiento jurídico dado por los ciudadanos le guste o no le guste pero esa es la realidad y esa es la realidad en la que nosotros vivimos es cierto que se está celebrando y ya solamente queda el trámite de elaborar

posiblemente proceso jurídico penal más importante que se ha vivido en toda la democracia de este país y este proceso por una serie de actos no de ideologías

no es cierto se están juzgando hechos concretos hechos cometidos por personas

no se está juzgando a ninguna institución no se está juzgando en ese procedimiento

o ideologías lo que se están juzgando son hechos hechos cometidos por personas que ocupaban determinados cargos en organizaciones cívicas o en instituciones elegidas democráticamente y que posiblemente se hayan podido a juicio de lo que han dicho las acusaciones del procedimiento saltar lo que es el ordenamiento jurídico vigente y como vivimos en un estado de derecho el que comete un acto que está recogido dentro del código penal está tipificado y que es contrario a la ley pues tiene que pagar las consecuencias o no le guste y entonces como no le gusta cómo funciona nuestro estado de derecho y como se ha celebrado ese juicio desde mi punto de vista con todas las garantías procesales que los ciudadanos nos hemos dado y que en otras ocasiones las esgrimimos las exigimos cuando nos interesa pero en esta ocasión las ocultamos

tenemos que acudir a determinados informes a determinadas pretensiones de organismos internacionales mire

referencia a un informe de naciones unidas eso no es un informe de naciones unidas

un informe de parte para que nos podamos entender todos es el que yo contrato para defender mis intereses yo pago en este caso bastante a un precio bastante elevado para que defienda mis intereses eso no es ni un organismo independiente ni es un informe objetivo es un informe de parte y fíjese usted ese informe de parte trata de analizar política y jurídica del estado español trata de analizar la situación de unas personas que están en prisión provisional y no hace ni el más mínimo de acercarse a cuál es la regulación de la prisión provisional en españa y si se cumplen o no se cumplen los requisitos que exige la ley porque si esa prisión es excesiva es arbitraria es innecesaria quien lo deciden en un sistema democrático y de derecho como es el nuestro son los tribunales

ya lo han dicho que la prisión provisional está perfectamente adecuada porque el artículo quinientos tres de la ley de enjuiciamiento criminal dice que una de las cuestiones fundamentales

penal es precisamente para evitar la huida del encausado del procesado del imputado del investigado para evitar la huida y del grupo de personas

han huido valientemente como unos héroes en el maletero de un coche

el ridículo pero no tienen la gallardía y la valentía de presentarse

claro el resto de los compañeros están en prisión provisional para evitar ese riesgo de fuga que no es un riesgo

hay unos cuantos que se han largado y como se han largado para evitar que eso

a derecho y eso no solamente lo digo yo lo dicen los tribunales españoles y caray algo que se les ha olvidado a los dos el tribunal de derechos humanos de estrasburgo

es correcta y que está ajustada a derecho y por lo tanto

una de las demandas de una de las personas procesadas en ese procedimiento pero me he ido mucho con el tema de los presos y me he dejado posiblemente

vista la fundamentación que hace usted de la moción que nos trae hoy aquí tenemos una idea y era algo que ya me suponía yo

que un parlamentario que pertenece a un grupo político legal dentro de un

en un estado democrático moderno suba aquí

usted desde el legislativo insta además no dice a quién no sabemos si tiene que suspender ese procedimiento

lo tiene que hacer el gobierno de la nación lo tiene que hacer el lehendakari que es a quien normalmente le instamos cuestiones políticas desde

eso es injerencia y eso es más propio de una democracia orgánica que de un sistema democrático moderno como el nuestro quizá porque a usted

que los sistemas democráticos modernos como el que vivimos y como el que defendemos el resto de los grupos
desde esta tribuna por eso vamos a votar en contra de su proposición muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna euskal sozialistak

buenos días pues señor urizar como ya preveíamos los socialistas tocaba este debate era de esperar nada que nos haya sorprendido precisamente

y hoy exactamente seis meses después este parlamento quiere dejarlo visto para sentencia

dar ya la sentencia desde el legislativo de lo que les corresponde a los tribunales independientemente de lo que cada uno particularmente nos merezca aunque la sentencia algunos parece que ya la tienen escrita de antemano que viene a ser o hacen lo que yo estimo que tienen que hacer

eso es lo que está haciendo reiteradamente euskal herria bildu un juicio paralelo desde el legislativo esa es la principal falla que tiene se lo ha dicho ya el señor arbulo

con valoración de pruebas aceptando o rechazando argumentos de testigos de unos sí de otros no en fin todo un ejemplo

en relación a la independencia de los poderes tampoco en esto me parece que estén ustedes para dar muchas lecciones a la población vasca vaya por delante porque luego en el debate nos distraemos con otras cosas que el grupo socialista reitera como lo ha hecho en cada ocasión que se ha planteado la oportunidad que reconocemos que en cataluña que es una sociedad extraordinariamente plural como la nuestra haya un problema político claro que sí y de convivencia y que es un problema dentro de cataluña

por los representantes elegidos por los ciudadanos mediante un procedimiento de negociación de pacto de tramitación y de aprobación con el máximo consenso siguiendo las normas y procedimientos jurídicos legales vigentes nada que no exista en cualquier país democrático del mundo algo que no se caracteriza precisamente

ni el anterior porque menos pacto acuerdo e intento de llegar aproximación con otros grupos ha habido de todo

que existe aunque muchos de los llamados independentistas lo nieguen permanentemente hay un problema serio también de relación entre cataluña y el resto de españa como puede haberlo con otras comunidades autónomas como puede haberlo con galicia

sean capaces de renovar el acuerdo que permita una mejor articulación territorial que perfeccione el modelo de éxito que ha sido hasta ahora el desarrollo de la españa descentralizada por eso queremos reiterar que esos problemas no se van a solucionar es verdad en el ámbito judicial ya lo sabemos pero tampoco despreciando las leyes como hacen muchos de ustedes ni las normas ni las decisiones adoptadas por los tribunales

porque ese es el principio básico de un estado de derecho ese que ustedes pretenden decir construir en solo una parte del territorio y hasta aquí la posición socialista

ni nos sintamos ajenos políticamente al juicio que se ha celebrado en los últimos tiempos va a tener derivadas políticas ese juicio lo que no sabemos es cuál es

es que el juicio no está siendo transparente se está transmitiendo en riguroso directo para todo el que lo quiera ver por lo tanto no hay nada que esconder no hay nada que ocultar

de las acusaciones o de la defensa pero no que se oculte la situación lo que no sabemos es si se acatará lo que establezca los tribunales o no sea lo que sea

porque si alguna reflexión tenemos que hacer al final de esta vista oral no es la de una tertulia mediática

cada defensa cada acusación o cada testigo haya dicho si para algo debiera de servir este debate para algo que supere la mera réplica de argumentos es para que uno se haga la reflexión de bueno y después de este juicio qué qué hacemos

que solo tienen que obedecer al pueblo como si el pueblo fuera una parte importantísima enorme de los catalanes es casi la mitad pero no llega y en el tramo final del juicio admitían sí que habían desobedecido pero solo un poquito la puntita nada más

lo que podía pasar en fin se ha oído de todo porque lo hemos podido oír y ver todos pero tal vez habría que plantearse si no hubiesen empezado por desobedecer a sabiendas de que lo hacían si hubieran empezado por otra cosa distinta saltarse la legalidad

y no habría venido lo que vino si hubiesen convocado elecciones como se les alentó

por parte de múltiples actores entre ellos el propio lehendakari como por cierto ha relatado él como testigo en el propio juicio

de lo que pasó después y de eso tienen que ser conscientes quienes están ahora mismo sentados en el banquillo

fuera de aquí y todavía se está a la espera de esa reflexión política estoy por oírle

alguna reflexión sobre si aquel movimiento que frustró la posibilidad de convocar elecciones y evitar otros

de aquello que pasó porque algunos tienen mucho que decir

en cataluña y no estoy hablando siquiera de argumentos de defensa jurídica allá cada cual cómo la ejerce si creen que es dando un mitin en un tribunal como hemos oído a algunos pues que lo hagan pero la sala no va analizar eso va a analizar si se produjeron o no determinados hechos si se hicieron o no con violencia

mi grupo puede tener una conclusión pero no nos corresponde y por lo tanto no vamos a entrar en valoraciones de posibles sentencias pero sí hemos observado lo que ha pasado como todo el mundo

y hemos observado que ustedes los representantes de pnv y de bildu han tenido la oportunidad de ofrecer su aliento a quienes son acusados allí mismo en el tribunal pero este juicio ha sido retransmitido en directo como decía antes

con minuciosidad y todos hemos podido ver y oír que se ha celebrado una vista con todas las garantías que se deben en un proceso judicial

que cuestione esta afirmación que los acusados se han podido defender como libremente han decidido

es verdad que son políticos que están en prisión y que han podido seguir ejerciendo su derecho a presentarse a unas elecciones a volver a pedir apoyo a los ciudadanos para defender las ideas que tienen independentistas y solo ese hecho ya desmonta el argumentario principal del proponente se lo recordaba bien el lehendakari al responderle la interpelación que da lugar a esta moción que esas personas

defendiendo las ideas que han querido defender han hecho campañas y han accedido a sus escaños acatando la constitución

y que estén enjuiciados lo es porque es una anomalía democrática

lo han hecho desde el poder establecido en cataluña que es lo que tiene que dirimir el tribunal a otros les ha pasado por otros motivos lo dije ya en la última ocasión una de tantas que debatimos sobre esto y lo repito hoy mi grupo entiende las diferentes opiniones que se pueda tener sobre los hechos

podemos compartir incluso las críticas a una situación de prisión provisional

que adopten los tribunales pero lo que no vamos a hacer es participar ni por activa ni por pasiva en una estrategia que persigue otra cosa socavar las bases del estado de derecho cuestionando un procedimiento judicial que ha hecho gala de garantías por todas las partes y que es el sustento de cualquier modelo de convivencia

el tribunal europeo de derechos humanos ha dicho que no admite ni siquiera la denuncia porque entiende que se han cumplido todos los requisitos legales para la celebración de ese juicio no y yo

observadores internacionales o relatores a los que usted hacía mención me recuerda

y no se reunía nunca ni con los socialistas ni con la gente del partido popular ni con las víctimas se reunía

de parte como el que ha hecho ese llamado organismo de las naciones unidas en cualquier caso

nuestra apuesta por el respeto el diálogo la negociación el pacto la pluralidad y la legalidad

o de los que se están estrenando en diputaciones y ayuntamientos no haya ni la más mínima tentación de arrastrar en sus decisiones a la población

ha abocado a su sociedad nos vale para ayer para hoy y es lo mismo que nos va a valer para el futuro nos parece una cuestión de principios por eso
vamos a votar en contra de su propuesta eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak egibar jauna zurea da hitza

politikoki vamos a descabezar líderes del soberanismo catalán y liquidar el independentismo eta jartzen dira ekimenak martxan

del soberanismo a modo de escarmiento evidentemente y por eso se espera ahora

para que nadie tenga ni siquiera no ya tentación ni duda de por dónde puede o no puede adentrarse el desarrollo político

el tema catalán es necesario rectificar no hemos sabido ni asimilar ni integrar a cataluña

el problema catalán no se puede resolver solo se puede conllevar

esa teoría que todavía es de aplicación o sea conllevar soportar

pero no resolver uno pide rectificar porque no han sabido ni asimilar ni integrar el otro pide conllevar

es única es indivisible no es parcelable y solamente emana del estado por lo tanto cataluña tendría que estar obligada a esa conllevancia ez da berria y en el debate que tuvimos aquí sobre esta materia

que también quedó aprobado en este parlamento que decíamos por dónde debe caminar una posible solución

lejos de ofrecer soluciones enquista bloquea y dificulta las mismas el conflicto político derivado de la relación entre el estado español y cataluña debe encontrar la solución dialogada y negociada por vías políticas y democráticas

a los distintos poderes del estado español a respetar el pueblo de cataluña a las personas que lo integran sus derechos individuales y colectivos

adopten sobre su futuro político hori da bidea para pasar de la conllevancia al respeto

señor urizar siento mucho haberle decepcionado pero mire la verdad es que uno da para lo que da y

y unos convencimientos y yo no quiero sacarle a usted

fantasmas del pasado como ha dicho es que los lleva usted dentro de la mochila si usted viene aquí solo ha hablarnos de presos políticos y yo cierro los ojos y veo a un tío de eh bildu hablando de presos políticos y confunde unos con otros

un flaco favor a las personas a las que se estaba refiriendo hoy a estos señores representantes ni del pueblo catalán ni historias

son representantes de sí mismos en un procedimiento judicial porque es que volvamos a hablar de democracia y no la orgánica que tanto le gusta

una parte de los ciudadanos de cataluña tienen un voto independentista

según el señor egibar es una amplia mayoría que históricamente ha ido demostrando

tiene una amplia minoría en este parlamento pues no falta uno si esa es una amplia mayoría de los ciudadanos de cataluña la suya es una amplia minoría del gobierno eso es faltar a la verdad señor egibar las cosas como son así de sencillo

y aquí se tiende a hablar todo el rato del respeto al pueblo de cataluña mire lo primero que tienen que hacer determinados políticos catalanes es respetar a los ciudadanos de cataluña

porque en cataluña no se respeta a todos los ciudadanos y eso es algo que en euskadi conocemos hemos vivido y hemos visto

y en cataluña no se está respetando a una gran parte de la ciudadanía de cataluña de los ciudadanos los pueblos

de esos derechos de los pueblos terminamos con esos conceptos del rancio nacionalismo de ese racionalismo antiguo de yo soy el pueblo yo decido quién es el pueblo

y qué categorías de ciudadanos tenemos dentro de este nuestro pueblo y eso es muy peligroso y desde luego lo que es desde mi punto de vista que puedo estar equivocado lógicamente

argumentos jurídicos en un procedimiento judicial lo que se tienen que

argumentos jurídicos y no hacer política

algunos se han equivocado y en lugar de contratar o pedir que su defensa la lleven letrados han buscado activistas de derechos y han querido hacer de un procedimiento judicial un escaparate político

va a ir en contra de sus propios derechos pero eso lo dirá la sentencia que nos guste o no nos guste tendremos que acatar digo yo por lo menos yo tengo la costumbre de acatar las sentencias me gusten o no me gusten o la fundamentación o el fallo

la misma eso es parte del sistema democrático en el que vivimos y en el que me gustaría mucho que de verdad aprendieran a vivir muchas gracias

cuando decía que esa foto fija que definen ustedes del régimen del setenta y ocho no es tal como no es tal la foto fija que quieren poner ustedes sobre el país vasco no es cierto todo se mueve todo es mutable todo es cambiable y efectivamente hay realidades nuevas en la política española y las hay también

está legitimado para hablar en nombre de todos ni de los vascos ni de los españoles y por supuesto tampoco

yo me voy a permitir también hacer una reflexión sobre cómo vemos nosotros de dónde surge este problema que estamos hablando aquí

y todo este movimiento independentista fue un momento independentista alentado y promovido por aquel

uno de los del tres por ciento que asustado por el enorme potencial de las movilizaciones sociales que se estaban dando en cataluña que se había convertido bajo su gobierno en el mejor laboratorio de los recortes sociales que podía pensar el pp tener nunca

como un caramelito para la población catalana vamos a dejar de hablar de esto que a mí me resulta incomodo

y vamos a hablar de una cosa que a los nacionalistas les pone mucho que es hablar de ensoñaciones y no bajar

y se apuntó al carro de la indignación ciudadana tratando de reconvertirla con cierto éxito por cierto en apoyo al movimiento secesionista como en españa todo va mal si somos catalanes nos va a ir todo estupendamente bien

que todos los nacionalistas han usado permanentemente y entonces empezó a hablar de lo que quería de lo que reclamaba de lo que ansiaba el pueblo catalán olvidándose de que por mucho que fuera gobiernos y por cierto con ese gobierno del señor mas

por esa misma historia es con el que gobierna esquerra republicana y al que ha apoyado la cup durante mucho tiempo esa misma cup bloqueó una sesión del parlamento catalán y a la que el señor mas pidió penas de cárcel para esos señores esos mismos con esas mismas contradicciones ha funcionado esta supuesta ambición nacionalista y con un tema que a mí sinceramente me ofende mucho es decir yo cuando desde el gobierno de cataluña se habla del pueblo catalán

y ninguno de ellos se siente representado por ese llamado gobierno catalán

con esos catalanes de los que habla el nacionalismo con esos catalanes que son habitualmente además la elite dirigente de cataluña

la burguesía catalana los menestrales los que han dirigido y los que han llevado adelante la riendas de la política catalana no ha sido el pueblo llano esto no ha sido una explosión de indignación popular

que lo empezó a ser y fue abortada por los llamados nacionalistas para dirigir esa indignación hacia otros territorios muy distintos y ahora tenemos una sociedad catalana

al cincuenta por ciento y una sociedad que está dividida al cincuenta por ciento

que por cierto no gestiona no legisla no gobierna no hace absolutamente nada en cataluña más que dedicarse a lanzar soflamas

y es un insulto para la mitad de la sociedad catalana y eso

independientemente de lo que usted quería traer aquí que era

y habrá que solucionarlo negociando claro que sí pero toda negociación también esta se hace de acuerdo a unas normas y a un procedimiento legal

está establecido y después se puede negociar políticamente para intentar cambiarlo claro que sí lo que no se puede hacer a sabiendas es saltárselo porque eso

tiene consecuencias y el que lo hace sabe que las va a tener luego no vale después sacar el paño de lágrimas

pero bien superada esta parte hay que abrir una etapa de diálogo y de negociación por supuesto con todos los catalanes no solo con los que se sienten independentistas por supuesto los socialistas estamos dispuestos por supuesto también

al que todos tuvimos acceso y que supone

cuando se ve y se articula toda una estrategia para controlar la sala segunda

de los procesos de ilegalización de los partidos y me hablan después de separación de poderes cuando hay un documento que demuestra fehacientemente la quiebra de ese principio eso por un lado yo cuando hablo del derecho a decidir

sobre las distintas opciones políticas que quieran trabajar desde el consenso o desde el acuerdo estamos hablando el derecho a decidir de la ciudadanía de cataluña no estoy hablando de un proyecto independentista que puede ser una de las opciones de ese derecho a decidir y cuando se está hablando del derecho a decidir no estamos hablando del cuarenta y nueve cuarenta y ocho por ciento de la ciudadanía de cataluña estamos hablando de muchísima

que ronda el setenta por ciento estamos hablando de ese porcentaje derecho a decidir horregatik nik ez dut

como ha sido un juicio absolutamente televisado y todo aquel que ha querido

hubo un momento en la declaración de turull que se adentró en una vamos a decir reflexión política y el señor marchena

diciendo eso no es relevante usted ya tendrá tiempo en el último turno para desahogarse fue la expresión que utilizó

tengo recogidas algunas de las frases de los acusados

que dice lo mejor para todos sería devolver la cuestión al terreno de la política de donde nunca debía de haber salido

romeva con la represión no van a convencer a los que apuestan por las vías pacíficas

somos juzgados como castigo al desafío política que representó la organización del referéndum sigo creyendo y defendiendo la libre determinación de cataluña

jordi turull el diálogo siempre debe ser el camino

había personas y ciudadanos no había miradas de odio sino miles de ojos brillantes soy independista y defiendo el derecho de autodeterminación

si la violencia policial no pudo con miles de personas una sentencia va a hacer que los catalanes dejen de luchar por su derecho a la autodeterminación

mi finalidad no es salir de la cárcel sino que saquemos una lección de la lucha de ciudadanos que no renunciaron a que su país pueda decidir su futuro

no tienen la solución al problema que les ha venido encima pero tienen la responsabilidad de no agravar la crisis política y finalmente

no estoy procesado por rebelión por el procés intuyo que es porque no he renunciado a mi actividad política no podrán impedir

que pretende que ellos mañana puedan vivir en un país mejor en una república catalana

kataluniak libre eta demokratikoki erabakiko du bere etorkizuna por eso quiero manifestar primero mi respeto y admiración

desde su posicionamiento inequívocamente pacífico democrático y político han dotado de contenido

al concepto de dignidad dignidad personal dignidad política y democrática alguien podrá

releyendo la sentencia cuando salga pues que

pero está claro que dentro de la historia de cataluña sí están haciendo historia creo que desde esa convicción el testimonio de ellos

y que cataluña tarde o temprano encontrará la vía para que lo que

de poder escuchar a víctimas de diferente signo de diferente victimización

a expertos en memoria política penitenciaria convivencia y toda esa escucha está aquí toda esa escucha está aquí porque de la escucha salen este tipo de iniciativas

es cierto cómo hacemos las cosas para que generen estos acuerdos si se habla previamente si se trabaja buscando un acuerdo

incluso en temas tan delicados como este y es posible y la importancia

baikortasunez lan egin behar dugu en el tema de los derechos humanos siempre se trabaja a favor de

siempre a favor siempre se hacen las cosas a favor de las víctimas y en este caso de las víctimas de la tortura

a favor de la justicia y a favor de la reparación y esto no es cosa de un grupo o de una persona esto es de todos y todas todos y todas las personas que estamos aquí hemos contribuido hoy a haceros y a rendiros este día que os merecéis pero de qué hablamos cuando hablamos de tortura la definición legal acordada a nivel internacional según la convención de las naciones unidas dice

todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves ya sean físicos o mentales con el fin de obtener de ella o

de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido

cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya

con su consentimiento o aquiescencia se trata de delitos complejos

marcos legales ineficaces sociedades poco sensibilizadas organizaciones de derechos humanos con pocos recursos autoridades que en el mejor de los casos miran hacia otro lado

con una formación deficiente y por supuesto y lo más importante un profundo error y horror ético que permite causar este injusto sufrimiento tolerarlo ampararlo o no combatirlo eficazmente

de la lacra de la tortura y euskadi euskal herria no ha sido una excepción

existe en todas aquellas situaciones en las que existen personas privadas de libertad

se crea un desequilibrio de poder donde la persona detenida depende totalmente de los individuos y de las autoridades responsables el riesgo es mayor

primero durante el periodo inicial de detención y custodia policial o también durante el traslado de un lugar de detención a otro o cuando las personas privadas de libertad están fuera de contacto de los demás detenidos

en los casos de detención en régimen de incomunicación o aislamiento tal es así que según amnistía internacional la detención bajo incomunicación

existe riesgo de tortura y otras formas de malos tratos dentro de cualquier instalación cerrada no solo en la cárceles y en las comisarías de policía sino también por ejemplo en las instituciones psiquiátricas

en los centros de detención de inmigrantes y en las zonas de tránsito en los puertos internacionales

en todas partes en cualquier país y en cualquier momento la prevención

es una estrategia global que trata de reducir este riesgo y de crear un entorno en el que existan menos probabilidades de que se produzcan

además de la de hoy otra proposición no de ley con el objeto de impulsar un proceso para la creación de un organismo

que establece el protocolo de estambul contribuya a la prevención de la tortura u otros tratos

de personas adultas y personas menores decía que euskadi no ha sido ni es una excepción

por supuesto durante la dictadura también ocurrió durante la transición

seguramente entre los grupos que vamos a apoyar esta iniciativa no nos pongamos de acuerdo en cifras sobre esta lacra pero con el tiempo voluntad

sería muy importante les voy a citar algunas cifras que pueden arrojar luz sobre esta realidad sentencias

condenatorias firmes veinte ratificadas por el tribunal supremo entre mil novecientos setenta y nueve y mil novecientos noventa y dos siete sentencias condenatorias por no investigar torturas entre dos mil dos y dos mil once

ciento cuarenta y cinco expedientes tramitados en base al decreto ciento siete barra dos mil doce

producidas en un contexto de violencia de motivación política entre mil novecientos sesenta y mil novecientos setenta y ocho y ciento noventa y tres casos consistentes analizados por el instituto vasco de criminología en base al protocolo de estambul y es que gracias a este estudio realizado por el equipo de paco etxeberria y

ha sido más que esporádica sino que está contrastado

una conducta reiterada en el país vasco tal y como dice el informe del ivac solo con sensibilidad frente al sufrimiento y la injusticia

también por estas víctimas junto con otras muchas que han sufrido las consecuencias de la violencia y el terrorismo en el país vasco se puede construir una cultura de derechos humanos

es un primer paso para mirar esa parte del espejo que ha formado parte de nuestro pasado y que no debería condicionar nuestro futuro como sociedad

víctimas reconocerlas reconocerlas en su sufrimiento reconocer que su sufrimiento es real

que fue injusto que nunca debió ocurrir el acuerdo unánime de hoy es una forma de reparar ese sufrimiento y esa injusticia y hacerlo no implica no reconocer otro tipo de injusticias

a la violencia de motivación política y en este sentido ha sido objeto de disputa de una disputa perversa

en este país se han utilizado para un perverso juego en el que se pretendían contabilizar unas víctimas para descontar

o para diluir responsabilidades éticas en graves vulneraciones de derechos humanos y nada más lejos de la realidad

y sea del tipo que sea su victimización porque sus sufrimientos se suman nunca se restan ni se descuentan ni se compensa

nos han enseñado los movimientos pacifistas y derechos humanos en este país es precisamente que no hay neutralidad ética ante una vulneración de derechos humanos por ello quisiera poner en valor el artículo publicado este año por cuarenta y tres víctimas de eta y de otras

considerando un error político y humano grave no querer reconocer a las víctimas del mal llamado abusos policiales y de grupos de extrema derecha algo que entendían pre político por encima de siglas banderas u opciones políticas concretas

mila esker y hay más referentes similares desde hace mucho tiempo

el debate de investidura de calvo sotelo ahí

también podemos recordar la carta publicada en el diario el país en febrero de mil novecientos ochenta y tres firmada por

fernando savater y josé ramón recalde en el que señalaban que

se practica la tortura en comisarías reformatorios y cárceles de manera frecuente y extendida proponemos

a quien corresponda y con el debido respeto la inmediata remisión a las cortes

año mil novecientos ochenta y tres carta escrita entre otros por fernando savater

pero además de esta dimensión de la tortura como una violencia de motivación política

otras víctimas en colectivos sociales especialmente vulnerables a estas graves conculcaciones de derechos humanos personas con discapacidad personas con enfermedad mental la población carcelaria las personas en situación de exclusión social el colectivo lgtb más o las personas migrantes por poner algunos ejemplos

no es algo solo del pasado es algo que interpela al presente y al futuro

una vez producidos no es positivo hacer comparaciones con otras vulneraciones de derechos humanos pero tampoco se pueden minimizar

no hay una neutralidad ética se debe realizar una crítica moral o incluso una autocritica por parte de las instituciones tal y como nos pide el ararteko porque si algo demandan las propias víctimas de la tortura es precisamente la necesidad de reconocimiento

desnudo y esposado me arrastraron por el suelo me golpearon los genitales las piernas y la cabeza con una porra pequeña me metieron una pistola en la boca llegando incluso a dispararla en un momento determinado uno me dio un golpe de kárate en el cuello

me resulta difícil de describir no eres nadie en sus manos cuando te la ponen queda algo de aire y puedes respirar en la segunda o tercera respiración el aire se calienta y de ahí en adelante sientes que te ahogas

otra encima algunas veces te ponen dos bolsas a la vez no sé cuantas veces se puede coger aire pero llega un momento cuando no hay aire cuando la bolsa se te pega a la cara

que la sueltan y vuelves a la vida otro testimonio si tuviera que describir la parte más dura de malos tratos más que los golpes que duelen diría

te parece que eres una cucaracha que no vales para nada y que pueden hacer contigo lo que quieran

y alguien te guía los golpes duelen y te dejan marca pero el acoso que tienes que te voy a matar que te voy a matar te voy a violar consigue que tú te lo creas y digas bueno aquí se acaba

estoy segura de que lo que te hacen mentalmente hace mucho más daño

que no se interprete como un intento de generalizar responsabilidades al conjunto de agentes de las fuerzas de seguridad el propio paco etxeberria reconocía que esto no tiene que ver con criminalizar a las fuerzas de seguridad porque la inmensa mayoría no se comporta así

conozco a la policía nacional a guardia civil gente que curra un montón

y es que sí no fuera también por un policía judicial en este caso jesús garcía que hizo correctamente su trabajo

identificado por lo tanto que quede claro que esta iniciativa no va contra nadie como he dicho al principio de mi intervención va a favor de toda la sociedad a favor de las víctimas por supuesto a favor de garantizar

y de los cuerpos de policía vasca porque la democracia se mejora y se refuerza esclareciendo estos casos y exigiendo a los poderes públicos que no miren hacia otro lado pidiéndoles que la impunidad deje de una vez por toda de ser la norma que no se justifique que no se niegue

las instituciones deben tener un control permanente sobre la tortura y perseguirla hasta las últimas consecuencias como un modo de prevenir eventuales prácticas irregulares

presta al conjunto de la ciudadanía desgraciadamente aún persiste una sensación de encubrimiento que no hace más que debilitar el estado de derecho cuando por ejemplo se otorgan indultos a reconocidos perpetradores

y a pesar de existir condenas judiciales y un detalle próligo del tormento al que fueron sometidas las víctimas beraientzat biktimentzat zeharo

muchas gracias presidenta lehendakari consejero consejera señorías

lógicamente en esta proposición no de ley cuando la señora zabala se puso en contacto conmigo ya hace

para aprobar esta iniciativa en los términos que ya nos había propuesto tal y como

el texto de la misma esta declaración y esta posición contra

forma parte de nuestras convicciones políticas de nuestras convicciones jurídicas de nuestras convicciones democráticas de nuestras convicciones éticas forma parte esta posición contraria ante todo tipo de tortura

un delito y su práctica repugna a toda persona con convicciones asentadas en el respeto a la vida a las personas al ser humano

es elemental su rechazo por parte de la sociedad democrática en este sentido el planteamiento que nos hace es asumible en el texto que ahora me voy a referir en la cercanía de la celebración del día

todos sabemos lo que pasa por el mundo todos contemplamos todos los días verdaderos casos increíbles de tortura por el mundo y desde luego ahí tenemos que estar todos juntos los demócratas unidos denunciarlos para hacerlos visibles para hacer esa labor también a la que usted se ha referido de prevención

lo tenemos instalado en nuestro acervo en nuestro ordenamiento jurídico la sociedad nuestra sociedad la sociedad española nuestro sistema jurídico asumió lo tratado en la convección contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes se celebró

del ochenta y cinco bueno se ha ido desarrollando ahí está o sea que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico desde luego que es necesario prevenir y que la sociedad establezca medidas también le tengo que decir

también discrepamos de algunas magnitudes o de algunas conclusiones de algunos informes

que hablan sobre el tema y que adoptan una actitud determinada en relación con algunas cuestiones y que no son probatorias de hechos

por concluyentes y en ese sentido tenemos esa capacidad de poder discrepar nosotros desde luego

a decirlo es confiar desde luego en el respeto en las sentencias judiciales en la investigación judicial y en lo que los jueces

y sobre todo lo que tengo que poner de manifiesto es nuestra perfecta estrecha íntima confianza

eso lo tenemos que decir porque es una íntima convicción y tenemos que manifestarlo así

pero nuestros posicionamientos han sido la garantía del cumplimiento de la ley la garantía de que las cosas se hagan bien la seguridad jurídica esa es el elemento fundamental que nos ha llevado a nosotros

pero que nada tienen que ver con el rechazo con la condena a la práctica de la tortura en cualquier parte del mundo tengo que decir

y discrepamos de algunos informes que se nos han planteado porque no nos ha parecido

suficientemente fundamentados en la necesidad jurídica y en el hecho incluso histórico pero en cualquier caso

bueno el debate hoy es otro porque usted no lo ha planteado

con tres partes y usted nos ha propuesto en primer lugar algo que asumimos porque ya lo habíamos hecho y porque lo asumimos con normalidad el parlamento vasco insta

el día internacional de apoyo a las víctimas de la tortura está claro que eso es bueno y es bueno y yo le agradezco que usted traiga este tipo de

nos gusta movernos en el orden internacional lo que naciones unidas en lo que la unión europea pide que conmemoremos

este tema en relación con la preservación de los derechos humanos es un elemento básico y fundamental y nosotros lo vamos a conmemorar cómo no vuelvo a decir recordando

en el ochenta y cuatro y españa al minuto uno de haberse celebrado y esa proclamación del día internacional de mil novecientos noventa y siete está claro que

con cómo la celebramos el objetivo dice la iniciativa

que supone esta clave vulneración de los derechos humanos efectivamente las víctimas

las víctimas de las vulneraciones de derechos humanos deben tener el reconocimiento que les ha llevado y lo vemos

su sufrimiento la necesidad de tener que huir que tener que refugiarse que tener que

que tener que pasar tantas privaciones prisión que morir incluso en relación con la práctica ese es

en cualquier caso no cabe ninguna duda vuelvo a decir forma parte del concierto internacional y tenemos que asumirlo y tenemos que adoptar

tengan que adoptar como referencia política y pública de los comportamientos y del respeto a los derechos humanos y está claro que también el enfoque

dice la iniciativa presentada el enfoque y contenido de los actos de conmemoración se adoptarán promoviendo el máximo consenso posible por los grupos parlamentarios bueno aquí estamos

vamos a ver vamos a trabajar lógicamente en esa labor de referencia de no

de prevención de una sociedad en relación

y con que no vuelva a producirse en la medida de lo posible eso está bien es una posición y lógicamente nosotros estaremos

se reconozca a las personas que sufren y a las personas cuyos derechos son vulnerados la conmemoración del día internacional que usted propone que se haga a través del gobierno vasco y de su actuación

la sociedad tiene que tener como es la cuestión que sirven estos días estos días señalados estos días que han sido asumidos por la inmensa mayoría de la colectividad internacional la sociedad tiene que tener conciencia clara de las vulneraciones de derechos humanos

y lógicamente ahí estaremos no hay más que leer lo que el rey juan carlos firmó en relación con el instrumento de ratificación de la convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles en diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro está ahí tiene que servirnos y nos sirve a nosotros en nuestro ordenamiento jurídico de guía de base de fundamento

está claro vuelvo a repetir que discreparemos de cuestiones discreparemos de instrumentos que se han empleado para descalificar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado o a la ertzaintza de eso discrepamos

entendemos que la actuación de la justicia la actuación de las investigaciones judiciales y de sus sentencias es el elemento fundamental y ha habido también

propaganda estrategias de negativización

de informes de actuaciones mal fundamentadas vamos a entender que hoy vamos a dar un paso adelante en lo que es reconocer desde luego las consecuencias

y vamos a ver cómo entre todos podemos hacer que eso en ninguna parte del mundo se vuelva a producir muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

gracias presidenta lehendakari consejeros consejera

buenos días a todas en torno a las víctimas de la tortura y abusos de poder no es ni la primera

en este parlamento y con ocasión de algunas cuestiones que ya han sido objeto de debate y han sido mencionadas

destinada a tomar medidas para satisfacer los derechos de verdad justicia y reparación y reconocimiento de estas víctimas los actos de reconocimiento

acto especial el día veintiséis de junio de apoyo a las víctimas de la tortura y abusos de poder que va a organizar en consenso con todas las fuerzas políticas del parlamento el gobierno vasco y otras instituciones vascas es específico los actos de reconocimiento en favor de las víctimas sean del terrorismo o de la violencia han venido siendo en este país más que un punto de encuentro un gran campo de combate es lo que le viene pasando también

y es una preocupación que sinceramente traemos los socialistas al debate de hoy y espero no llevarme de verdad después de que se produzca la aprobación por unanimidad

proposición no de ley con respecto a la justificación y razón ética democrática y política el apoyo de mi grupo está más que justificada

y los abusos de poder es un sufrimiento injusto como el del resto de víctimas merece todo el apoyo y consideración

de toda la sociedad vasca a través de sus instituciones no hay razón ni justificación ni contextualización que amparara las torturas los abusos policiales

a estas víctimas de torturas y abusos la violencia sufrida por estas víctimas

decente porque en una sociedad democrática decente la aceptación y el respeto de los valores y principios que inspiran el estado de derecho deben ser indisponibles y el respeto a los derechos humanos un deber y una obligación irrenunciable cuando se conculcan los mismos comprender e interiorizar esto asentarlo en toda la sociedad vasca es un trabajo que tenemos aún pendiente

e interiorizar de manera nítida que los derechos humanos son de todas las personas no existen los nuestros porque también lo son de aquellas que son distintas a nosotras y que piensan diferente creer en los derechos humanos

que no han respetado los nuestros o que los han vulnerado o que nos han hecho daño admitir que se trasgreda esa línea en determinadas circunstancia

es algo que no se puede permitir ninguna sociedad insisto que se considere decente en términos democráticos condenar el terrorismo de eta el gal y el batallón vasco español y no condenar las torturas y los abusos de poder además de profundamente incoherente éticamente insostenible y absolutamente antidemocrático igual que lo es reconocer la injusticia del sufrimiento de las víctimas de las torturas y los abusos y no hacerlo con las víctimas del terrorismo lo mismo nunca ninguna de estas agresiones estuvieron

nunca fue legítimo ni antes ni ahora cuando hablamos de derechos humanos en nuestro país hablamos muchas veces en compartimentos estancos los derechos

estableciendo situando en compartimentos estancos somos mucho de trabajar

y trabajar un poco en un mundo muy sectario en el que hemos encasillado a las personas en extremos reforzando siempre nuestras diferencias y sin embargo la realidad nos ha dado la razón en que somos tremendamente complejos también los y las vascas y nos movemos

gran y variada gama de grises creo que el trabajo está en romper

a todas las víctimas sean de verdad y sean hechos como un duelo colectivo de toda la sociedad vasca porque

hay veces que reclamamos el olvido de unas cosas y la memoria de otra y al revés las razones en contra del olvido de unas y a favor de la obligación de recordar a otras es un paradigma del pasado de las trincheras los compartimentos estancos y el sectarismo las víctimas

víctimas responsabilidad de todos y de todas sino presencias a veces un poco incomodas sobre quienes recaía la sospecha de haber merecido su suerte ha habido silencios muchos silencios cómplices silencios impuestos y silencios escogidos ha habido también silencios

o la indolencia muchas veces pero esto tiene que ver mucho con las fronteras que nos hemos construido uno veía a la otra

o como una víctima que es víctima pero con la que no quiere tener nada que ver cada uno mirando al resto como si fueran los otros y tenemos creo

de romper esos patrones por eso debemos de trabajar por configurar esos actos de reconocimiento

y un poquito más de verdad mucho me temo que aún estamos lejos de romper todos los patrones

el día de la memoria sigue estando lleno de silencios tenemos un día de las víctimas del terrorismo ahora apoyado por todas ahora vamos a tener un día en apoyo de las víctimas

y no les ocultaré mi temor si individualizando como estamos haciendo en actos de reconocimiento a las distintas víctimas no vamos o estamos funcionando mucho en esos parámetros del pasado o no nos dejamos a alguien olvidado porque dónde están las víctimas

para las de la tortura dónde están las de la violencia de persecución dónde podemos incluir a eduardo moreno bergaretxe pertur a josé miguel etxeberria naparra a humberto fouz a jorge garcía y a fernando quiroga

ni reconocidas en qué homenaje dónde se van a sentir esas víctimas más cómodas solo digo que

podemos decir que sí a los actos de reconocimiento pero luego hay que afrontar con valentía el contenido y las palabras y el apoyo de esos actos de reconocimiento hay gente que piense

y a aquellas otras que las entendieron o justificaron cuando no las aplaudieron

que crean que soy de la ley del ojo por ojo y que entendí comprendí sigo entendiendo que en un momento dado existieran

terroristas que respondieron a eta con más horror incluso que crea que justifico

e incluso habrá gente que piensa todo lo contrario que si no siento esto

pues creo que ninguna conocen a los socialistas vascos y a mí tampoco quiero decirle que vitalmente llevamos mucho tiempo de dolor desde las cárceles franquistas y su tortura a la posterior de eta que he visto sufrir muchísimo muchísimo

no lo voy a contar aquí y que en toda esa travesía personal siempre he hecho lo posible por mantener dos principios

y haber estado siempre del lado de la no violencia nunca me he propuesto odiar y si lo hice en algún momento

y que eso no es fácil no es fácil no dejarse llevar por el odio rencor y la venganza y que deja heridas todas dejan heridas

pero puedo decir que no odio que no tengo rencor que no quiero venganza que no entiendo comprendo justifico jamás ningún sufrimiento causado por la violencia o el terrorismo

rechazables y condenables porque la violencia que sufrieron

del estado que les debieron de proteger y garantizarles sus derechos es inadmisible e injustificable en cualquier circunstancia y lugar

estaremos en los actos de reconocimiento público de las instituciones vascas por eso votamos a favor de esta proposición no de ley sin excusas ni justificaciones sin más no se trata del dolor y el sufrimiento del otro nos ocupa la responsabilidad de estas víctimas que son de verdad creemos de todos muchas gracias

hoy vamos a proponer con esta iniciativa la celebración del día internacional de apoyo a las víctimas de la tortura y me preguntaba cómo ofrecerles apoyo a las víctimas de la tortura no creo que las víctimas vascas

tenga la expectativa de que sus torturadoras torturadores cumplan penas larguísimas y en condiciones inhumanas las merecerían pero no creo que tampoco las víctimas de la tortura reclamen altísimas compensaciones o indemnizaciones no creo si quiera que quieran una declaración

vacía de condena por cubrir el expediente sino que creo que les basta con que se les sostenga la mirada y se les diga que lo que sucedió es cierto que el testimonio que dan es veraz

es verdad que se les mire a los ojos y se les diga con sinceridad os creemos

a quienes se ha privado incluso de su mera existencia durante años no existieron eran

eran fruto de manuales de terroristas eran una coartada política su tragedia era inexistente mera ficción con oscuros intereses simplemente una mentira tal vez la mentira más sofisticada y elaborada de la historia

fenómeno que se produce cuando un segmento de la sociedad a menudo luchando con el trauma del cambio

confortable da la espalda a la realidad en favor de una mentira que le es más confortable muchos han dado

estaba lejos de ser esporádica o incidental en españa el comité contra la tortura ha tomado en consideración quejas individuales por falta de investigación en el caso de encarni blanco que se encuentra hoy con nosotros o las torturas denunciadas por orkartz gallastegi detenido por la ertzaintza

kepa urra al que se le reconoció que se vulneró su derecho a la reparación al indultarse a sus torturadores el comité de derechos humanos ha condenado a españa por practicar torturas en el caso de juana atxabal o más recientemente hoy exactamente hace un mes

bermatzeko hoy quiero resaltar que efectivamente más allá del reconocimiento social que ya tenían las víctimas de la tortura

vamos a avanzar en el reconocimiento institucional y esta iniciativa lejos de ser la meta nos debe impulsar a seguir trabajando

y ofrecerles todo el reconocimiento y reparación que merecen para ello es preciso seguir

en la imposición de castigos en la audiencia nacional esas autoinculpaciones o incriminaciones a terceras personas

imputaciones irregulares condenas arbitrarias la famosa teoría del árbol del fruto envenenado la verdad judicial la oficial esa que ha venido a instaurar la audiencia nacional está contaminada

en la extensión que ahora estamos evidenciando tenemos pendiente completar

todos los testimonios de quienes han sufrido esta tragedia y dotándolos de credibilidad por medio de instrumentos científicos como el protocolo de estambul

encontrar un marco legal adecuado todavía a día de hoy inexistente ya que esa ley que hemos aprobado hace poco de víctimas de vulneraciones de derechos humanos todavía

y restitución de las personas torturadas tenemos que introducir mecanismos eficaces de prevención que impidan que estos hechos vuelvan a reproducirse y efectivamente

alto nivel institucional consensuado por las fuerzas políticas para visibilizar el reconocimiento y reparación institucional

que coincida con el día internacional de apoyo a las víctimas de la tortura

no tanto su contenido sino la unanimidad en su respaldo el contenido sí es un avance más en una postura reiterada y constante en este parlamento vasco

y defensa de la legalidad internacional y los derechos humanos la novedad sin embargo es que por primera vez

va haber una votación unánime en esta cámara en una iniciativa relacionada con la tortura

que hoy nos sumamos en pleno a la iniciativa de naciones unidas de conmemorar en euskadi el día internacional

el próximo veintiséis de junio este es un salto cualitativo en el camino del reconocimiento a unas víctimas silenciadas y negadas en muchas ocasiones

por ser precisamente cometidos por quien tiene encomendada la protección y defensa de los derechos básicos de la ciudadanía de todas y cada una de las personas sin excepción

gozan de los mismos derechos a la verdad la justicia y la reparación establecidos por la legalidad internacional para las víctimas son víctimas víctimas con mayúsculas

no de ley aborda el reconocimiento a estas víctimas como parte del derecho a la reparación honen harira pili zabala legebiltzarkidearen lana

horrela eskatzen dute nos queda camino por recorrer camino para seguir construyendo un país comprometido con los derechos humanos y la dignidad de las personas

la legislación internacional y la interna establecen mandatos claros a los poderes públicos deben actuar con absoluta contundencia contra la tortura no es una opción es un mandato legal

la tutela judicial aun siendo necesaria no es suficiente la administración

y debe adelantarse con actuaciones preventivas la grabación audiovisual de la detención

los exámenes realizados por un médico de confianza la comunicación a la familia de la detención y del lugar donde

son medidas de obligado cumplimiento son medidas además que ayudan a prevenir la aparición de malos tratos y torturas son medidas que recomienda el comité europeo y otros organismos internacionales medidas preventivas que debemos hacer efectivas

hoy es el día del acuerdo y con eso quiero quedarme

de invitación a seguir trabajando por el acuerdo necesitamos más acuerdos como el de hoy pronunciamientos claros y unánimes sobre lo injusto del daño causado por el terrorismo

merece la pena trabajar esos acuerdos tenemos que seguir dando pasos en un camino que necesariamente hemos de recorrer juntos

pasos con acuerdos que entierren definitivamente la actividad terrorista

que construyan una convivencia basada en la memoria de lo sucedido la dignidad de las víctimas lo injusto de la violencia

esta es la invitación unánime que hoy recibimos merece la pena trabajar esos acuerdos y seguir dando pasos juntos eskerrik asko eskerrik asko iturrate jauna

a pesar de lo que aquí hemos oído me quedo con el consenso

y sé que todavía existen muchos negacionismos todavía un poco en el aire por parte de diferentes personas

hacia las víctimas de la tortura negacionismo hacia las víctimas de eta eso ha existido

rafi todo eso que has expresado

que te miren con muchísima desconfianza por defender a personas que han sufrido por pensar que yo no las puedo entender

intento ponerme siempre en el lugar de la víctima siempre en el lugar de la víctima eso sí se necesita una verdad objetiva los informes científicos objetivos realizados con absoluto rigor histórico existen están sobre la mesa

gracias presidenta mire señora zabala habla usted de consenso bien vamos a ver que

ha presentado en relación con el día internacional y con algunas cuestiones con un posicionamiento de esta cámara

en esa reunión que tuvimos hace unos meses o hace unas semanas para hablar de esta iniciativa suya y que estábamos dispuestos

en muy buena voluntad que alguien nos iba a insultar

y eso es lo que ha ocurrido señora zabala

en este debate pero mira la novedad no ha sido esa

y que se nos agrede alguien ha hablado aquí de denunciar la postura del partido popular denunciar

hablando de una cuestión que nos estamos posicionando denunciar

a quienes condenamos la tortura a quienes dijimos de celebrar el día a favor de las víctimas que han sufrido tortura

a quienes exigimos que se investiguen los casos de tortura a quienes exigimos que los responsables de tortura sean juzgados y condenados

que venimos aquí con la buena voluntad que usted me pedía y que yo se la di para venir aquí

pues tenemos que aguantar lo que ya conocemos lo que ya conocemos que es el insulto y que es esa descalificación

cuando hacemos un planteamiento exigentes nosotros décimos cómo vamos a acudir a la ponencia de

en esta cámara y por quién y quién nos insulta

quién nos insulta nos insulta quien no puede sacudirse de la órbita del mayor torturador que ha habido en este país que ha sido eta

la principal fuente de tortura de este país en relación con personas

con esposas con maridos con amigos

para reconocer esto se nos insulta es decir quien ha venido aquí a tratar de dar lecciones de qué nos puede dar lecciones ese portavoz aquí

usted me dijo que no se nos iba a insultar usted me dijo que íbamos a hablar del día internacional

no me dijo toda la verdad y se nos ha venido a insultar pero digo nosotros

conmemoramos el día de las víctimas de la tortura pero hay un grupo parlamentario que no condena

que no condena la tortura de eta la tortura que ha sufrido tanta gente en este país que conocemos

compañeros se han sentado aquí con nosotros y han sido torturados han sido asesinados por la banda terrorista eta o sea que yo soy el hipócrita yo soy el fraudulento yo que condeno la tortura

lo he hecho y yo tengo que venir a aguantar eso diga usted que las iniciativas

propuesta yo se la sumo por qué no presenta una iniciativa exigiendo lo que exige para que estos voten si la presento yo me van a insultar otra vez

por qué no la presenta haga esa reflexión habla que quiere conseguir

con propuestas de consenso esto no es buscar el consenso señora zabala

yo le digo que siento siento que

y siento que no haya sido capaz de neutralizar desde luego los insultos a quienes más hemos sufrido

aquí ha habido compañeros que ya no están muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak romero

yo hago mi discurso yo tengo mi posición no intente trasladar la responsabilidad a la proponente

a tener yo tengo mi propia posición vote como quiera

como me dé la gana usted dice insultos y agresiones pero yo lo único que he hecho es una crítica que creo que es para eso para lo que está este atril

enfrentarse a posiciones que entiendo son hipócritas y fraudulentas y le voy a explicar por qué el primer fraude lo comete cuando usted dice

reconocer nada que ese es el problema y que es eso lo que yo le estoy achancando artículo uno de la convención contra la tortura

son esto y de esto estamos hablando y usted tiene que recurrir a eta porque está muy incomodo con el tema este que estamos debatiendo y yo le tengo que decir una cosa no niego ningún de violencia no niego a ninguna víctima de ningún tipo de violencia tampoco de la de eta no niego ninguna forma ninguna intensidad ningún tipo de sufrimiento quiero que todo el mapa de todas las

esté encima de la mesa para poder comprobar lo que ha pasado en este país en toda su

porque aquí está el segundo fraude usted habla

no reconoce la existencia de víctimas de la tortura en este país habla del mundo en cualquier parte del mundo porque usted tal vez denuncie la tortura pues no sé en turquía en congo o en corea del norte

es que están aquí mismo y solo piden que se les mire a los ojos y que se reconozca que el testimonio que dan

que ellos tienen sea igualmente reconocido y así entiendo que lo que ustedes quieren hacer es asumir fraudulentamente el día sin víctimas de la tortura para poderse reforzar en su relato

de que el estado en ningún momento incurrió en ningún tipo de vulneración de derechos humanos de que no existe ninguna responsabilidad achacada al estado achacada a ustedes por ningún tipo de vulneración de derechos humanos y entre ella por la propia

gracias señora presidenta señor lehendakari consejeros señorías la proposición no de ley que presento en nombre del grupo popular hace referencia

dos mil diecinueve no ha llegado a la cámara este proyecto de ley de modificación

interpelamos a la señora consejera la señora consejera nos explicó el trabajo iniciado para dar cumplimiento a este compromiso

era mayor que lo que pretendía inicialmente la iniciativa y que requería de una nueva ley y no de una modificación nosotros compartimos plenamente

cambio de criterio por así decirlo porque efectivamente después de veintiuno años es preciso una actualización integral mucho más completa

esa propuesta del gobierno de hacer un proyecto de ley nuevo porque efectivamente los retos actuales a los que debe

requiere incorporar todas las modificaciones que se han dado tanto en la actividad agraria como en el desarrollo territorial donde confluyen todas las políticas sectoriales que afectan a un mismo entorno y donde

atendiendo a las nuevas realidades es preciso también imprescindible desde nuestro punto de vista una nueva definición de los objetivos

e institucionales también hay que tener en cuenta los retos de futuro que afectan al medio rural es muy importante revisar las zonificaciones rurales definiendo las tipologías y los instrumentos de planificación que afectan las zonas de montaña qué características tienen y cuáles son las medidas que se deben de implantar en esas zonas por lo tanto la

y eso también como decíamos desde el grupo popular hay que modificarlo transformarlo y eso también afecta esta ley

de las políticas de desarrollo rural es necesario actualizarlas fortalecerlas en la medida que

formados por representantes de la sociedad de ámbito de esas zonas de esas comarcas para que surjan las iniciativas de abajo hacia arriba con una amplia representación del tejido social de cada comarca que luego a su vez también son quienes van a desarrollar de alguna manera los planes de desarrollo rural local con lo cual formarán parte

de euskadi del país vasco entonces todas estas estructuras requieren también de un papel importante

a cómo fortalecer estos grupos de acción local para que realmente puedan trabajar con aquellas iniciativas que se presentan en las comarcas a nosotros esto nos parece muy importante hablábamos hace pocos días en esta cámara de

aquí es donde realmente en estos grupos de acción local y en los planes de desarrollo local es donde realmente se pueden incorporar iniciativas específicas de cada zona de cada comarca del territorio que son muy diferentes y para eso la ley de desarrollo rural

nuevas competencias para estas estructuras y nuevas actividades

coincidíamos con la señora consejera en la necesidad como les decía de esos instrumentos de gobernanza más eficientes

periodo de desarrollo de esta ley y hemos hecho

un poco de aglutinante y que supervisaba

leyes decretos que afectan al ámbito rural pasasen por landaberri y fuesen informados si realmente tenían alguna acepción negativa o tenía alguna pega aquel

esto ha sido muy difícil ha sido muy complicado de gestionarlo que cualquier

órgano más añadido lo que ha hecho que en muchísimas ocasiones el informe de landaberri no se incorporase

por lo tanto no hemos cumplido por lo tanto con la voluntad de la ley y para eso tenemos que hacer una estructura

de estos órganos de gobernanza órganos de gobernanza que nos tienen que dar la posibilidad de un desarrollo de la ley mucho más eficaz

servirán pues como les decía para correcta aplicación del programa de desarrollo rural

una ley de desarrollo rural que se modifique que se haga una nueva pero es que

el plan de desarrollo rural de euskadi el plan de desarrollo rural para el país vasco estos programas

que surgió de la necesidad de apoyar al que llamamos el primer pilar de la paz

a las actividades de producción este programa de desarrollo rural actualmente es el dos mil quince dos mil veinte del país vasco

millónes de euros para este periodo de ayudas europeas no es una

es una iniciativa que va a dar cobertura actualizada a los planes de desarrollo rural por lo tanto estamos yo creo que ante una ley que tiene mucha fuerza que puede gestionar que puede ayudar a enfocar el desarrollo rural de una manera mucho más acorde a la realidad porque estos planes contienen las prioridades del país vasco en lo que se refiere

que se contemplan estos se desarrollan mediante ejes y medidas para ir desarrollando en estos periodos de desarrollo rural si nos referimos al actual que es dos mil quince dos mil veinte el montante económico total de este plan de desarrollo son doscientos noventa millónes de euros como les decía ochenta y siete millónes de euros creo que son

y ciento cincuenta y tres millónes de euros de complementos adicionales de la financiación

se trata por tanto de cómo abordar los desafíos y oportunidades a los que nos enfrentamos en el ámbito rural y tenemos el presupuesto y tenemos los ejes las medidas y para que esto tenga una mayor

pues debemos contar con una estructura de gobernanza que nos ayude a ello

creemos que esta ley debe de recoger los órganos de gobernanza de manera que puedan ser eficaces por eso nosotros desde el grupo popular tal y como lo expresamos

que después de veintiuno años exista una nueva o se

acorde a la realidad del medio rural actual a abordar

a las que nos enfrentamos y por eso presentamos una iniciativa que aparentemente es sencilla

importantísima para el ámbito rural y que es muy importante que se actualice

a gestionar el desarrollo rural y poder llevar todas esas iniciativas que expresamos aquí de manera tan reiterada que son necesarias y por lo tanto

enmiendas yo espero contar con el apoyo de la cámara para que esta iniciativa salga adelante y podamos

el desarrollo la aplicación de los planes de desarrollo rural y la ejecución de todas las medidas que en el ámbito rural se puedan aplicar o consideremos necesario aplicarlas

presidenta señorías señora lópez de ocariz compartimos su iniciativa estamos de acuerdo con que hay que actualizar la ley de desarrollo

en estos momentos y mirando al futuro lo es mucho más porque en cierto modo es un agente decisivo para combatir algunos de los desafíos

el conjunto de la humanidad el problema del despoblamiento el problema de las concentraciones en las grandes ciudades la defensa del medio ambiente

que constituyen ahora mismo que constituyen ya junto con el cambio climático

para los próximos veinte o treinta años en relación a poder dominarlos a poder controlarlos a que la actividad humana pueda ponerle freno a esos grandes problemas y encauzarlos de otra forma o a que se nos vayan

en estos momentos replantearse como ya estaba previsto en el calendario

la actualización de esta ley de desarrollo rural nos parece correcto además el propio gobierno ha manifestado su interés de hacerlo en este año y además ha señalado ya en el anteproyecto en las líneas generales que planteó para

criterios sobre la participación criterios sobre la financiación en fin criterios en muchos ámbitos es evidente que

de una planificación en el conjunto de las políticas sectoriales que necesita de un apoyo de una aportación por parte de las instituciones en la vivienda

en la sanidad en la educación en la movilidad en fin en muchas cosas

para poder hacerlo es cierto que hay que buscar también un equilibrio entre lo que es

y que de alguna forma esto también se ha ido un poco desproporcionando

habrá que revisar también ese planteamiento es evidente que está cambiando la política comunitaria por las circunstancias

rural fundamentalmente en su financiación y también en sus

estamos además en un periodo en el que se tiene que volver a discutir los presupuestos de la unión europea y donde tendrá que salir la nueva financiación de la política agraria común que genera obviamente

fundamentalmente en relación con el brexit en fin hay muchos elementos de política general de política internacional y también de política local

posicionarse nos parece por tanto razonable esta iniciativa por eso no hemos presentado ninguna enmienda creemos que

un poco más sobre el gobierno para que esta ley llegue

curso en este año nos parece razonable y por eso la votaremos a favor muchas gracias eskerrik asko

guztioi egun on coincidimos con el grupo proponente con la proponente de esta iniciativa en la importancia de la ley de desarrollo rural en un debate que hemos tenido recientemente el mes pasado hablando del despoblamiento del mundo rural y de las causas yo hacía referencia a que

derivadas de la imposibilidad de tener una buena calidad de vida una estabilidad económica o una compatibilidad laboral y familiar en el mundo rural

no han sido suficientes porque no basta con dar dinero no basta con construir carreteras y no basta con hacerles llegar

mal entendido sino que la población que vive en el mundo rural necesita políticas de vivienda políticas educativas políticas sanitarias o de infraestructuras también

por eso cuando vemos la ley que tenemos ahora en vigor del año noventa y ocho de desarrollo rural y vemos que además de los objetivos generales habla de objetivos sectoriales ligados a la diversificación del tejido económico la ordenación del territorio

la ley de desarrollo rural es un instrumento

al desarrollo de ese mundo rural también los programas de desarrollo rural que nacen de esa ley que ella misma establece el procedimiento para su

como he dicho a lo largo de mi intervención el dinero es una herramienta que nos permite

que cada grupo buscamos o que como país deberíamos de buscar pero el dinero es una herramienta no debe convertirse en una meta y la misma

en sí misma no se trata de aprobar la ley de desarrollo rural per se

sino qué modelo buscamos con esas ayudas y con esa ley de ahí que veamos con buenos ojos la iniciativa del grupo popular cierto que es insuficiente pero

el dinero que se utiliza para el desarrollo rural es un dinero público y por lo tanto es fundamental que haya unos mecanismos de control

de garantía para ver a quién se le da cómo se le da y qué hace con ese dinero por lo tanto vamos a apoyar nuestro grupo también la propuesta aun teniendo en cuenta que los plazos que se plantean en el segundo de los puntos seguramente serán difíciles de cumplir porque el gobierno

haciendo gala de su poca diligencia va retrasado también en este tema en esta materia pero en cualquier caso no está demás y es importante y ya lo hicimos

ese proyecto de ley cuanto antes y completo para que pueda posibilitarse el debate

de que sea demasiado tarde y pase otra legislatura sin que tengamos esta ley tan importante gracias eskerrik asko becerra jauna eh bildu taldearen ordezkaria

han pasado ya veinte años desde que esta ley se presentó yo creo que andamos un poco tarde porque además no es una modificación de ley sino que es una nueva teníamos que reconocer que era necesario han pasado también dos años desde el último documento estratégico con esas nuevas líneas pero ya han pasado dos años dos años desde que se planteó el borrador otra vez yo creo que como poco vamos de manera un poco lenta también han pasado quince días desde que debatíamos el tema de la despoblación aquí mismo

así ha sido así que de momento creo que estamos a tiempo estamos a tiempo de debatir el anteproyecto pero también de seguir pidiendo que la nueva ley de desarrollo rural

de este año el diagnóstico yo creo que todos los tenemos claro y además hace quince días lo debatimos aquí entre todos y todas es verdad que las formas no fueron las mejores y es verdad que la proposición inicial base lo que salió fue bueno pues

un sí es no es no pero no se vio claramente la necesidad del cambio de poner esta ley encima de la mesa

o el medio rural absolutamente necesaria y esencial

que estemos de acuerdo en que el medio rural se vacía yo creo que eso nadie lo pone en duda

que falta servicios bueno que tenemos que ruralizar

y que hay que defender la tierra ese es el diagnóstico en treinta segundos y yo creo que en ese podemos estar de acuerdo pero no todo vale quiero decir podemos seguir aquí debatiendo podemos seguir aquí metiendo proposiciones no de ley pero faltan pasos y faltan pasos porque decía yo arrancaba con el tiempo es que han pasado veinte años es que nos disolvemos en el tiempo

que mientras la semana pasada pensaba que esta proposición no tenía mucho sentido debatirla hoy pues después de oír la interpelación y la respuesta de la señora consejera entiendo que no solamente es necesaria sino que pues que encima

que podría sobrar el debate pensaba pues no me equivocaba no sobra el debate y creo que no va a sobrar

bueno yo creo que reconocía reconocía un montón de cosas decía que no era suficiente la modificación de la ley efectivamente que la ley estaba caducada así lo planteaba que el proceso estaba siendo lento porque bueno había contado con todos los agentes y es lo que se debe hacer efectivamente

yo casi me quedo con la última frase con ese compromiso por acelerar los plazos bien esta semana el lunes por la mañana nos encontramos el anteproyecto encima de la mesa a mí lo que así a primera vista me pone es en alerta en alerta porque veo un anteproyecto como poco que me preocupa

vemos como de repente desaparecen herramientas como crean nuevas herramientas no sé sabe muy bien si para controlar o no

pero la sensación de centralización de control y de no dejar hacer a los agentes eso de endógeno creo lo entendemos justo al revés en vez de abajo hacia arriba lo entendemos de arriba hacia abajo y entonces a mí preocupa un poco cuando he visto el anteproyecto en esa cosa de mí pensar en los tiempos pues tenemos un mes

creo que están a tiempo y es más yo les pedía desde aquí por favor que alguien haga algo

lo que tenemos encima de la mesa con la nueva ley de desarrollo rural bueno yo qué le voy a decir a final de año

porque al final de año es que yo ya veo que estamos a final de la legislatura no sé si antes o después pero me da la sensación de que vamos a pegar un salto a la siguiente

los objetivos yo creo que estamos de acuerdo en que son compartidos al que todo el mundo que está en esta cámara nos preocupa cómo está el medio rural y el sector primario pero yo creo que las formas y las herramientas incluso la capacidad de los órganos de gobernanza de actuar pues no sé si la visión es la misma yo ya voy a empezar pensando en que la ley de desarrollo rural

conceptos que se usan tanto que casi están perdiendo ya un poco el valor y el sentido por sobreuso nada más

pero también el sector primaria desde luego como primer gestor también se mantenga pero también como garantía para que la parte urbana sepa que está ahí

así que yo creo que hay que invertir en cohesión rural lo tengo absolutamente claro además tiene que ser un objetivo prioritario de la ley en el ante proyecto nombra una y otra vez la cohesión

a la práctica el objetivo de esta ley dotar de recursos esenciales

única fórmula de garantizar que ahí en los pueblos vamos a quedar alguien desde luego voy a ir acabando esta ley nos trae oportunidades efectivamente

por delante lo decía en el debate de despoblación además yo creo que hay que presentar una estrategia de país es que no lo entiendo de otra manera además una estrategia de país para que el medio rural esté en igualdad que el resto del territorio tan sencillo que no sea de segunda división

efectivamente hay que contar con todos los sectores pero el medio no puede dejar de contar con el sector primario

así que mi planteamiento es que hay que empoderar a lo rural como garantía de futuro también y bueno en principio nosotros no hemos metido enmiendas estamos de acuerdo

yo creo que lo habíamos debatido hace quince días repetir por repetir los debates tampoco sirve de nada así que con eso me quedo bukatzeko

resulta evidente que es preciso adecuar los equipamientos y servicios indispensables como es el caso

de empleo y escasez de las rentas derivadas de unas economías centradas en el sector agrario suponen un obstáculo fundamental para la propia pervivencia del medio rural y por ende de la multifuncionalidad que desarrolla a favor de la sociedad vasca el desarrollo integral

de limitada extensión geográfica y elevada densidad media de poblacion que cuenta con un nivel significativo de desarrollo económico general además

en algunas de nuestras zonas rurales lo que genera algunos inconvenientes pero a la vez presenta aspectos positivos esto que he leído no es mío no es mío en el preámbulo de la ley de desarrollo rural de mil novecientos noventa y ocho que termina diciendo a tal efecto

a la vez que se debe desarrollar una discriminación positiva de carácter general que permita ponderar la utilización de criterios de naturaleza económica o de umbrales mínimos de población para la provisión de los equipamientos básicos para ello es evidente que se precisa del esfuerzo del conjunto de la sociedad vasca

la presente ley intenta dar satisfacción a la necesidad de articular los instrumentos

permitan la proyección coordinada de las políticas sectoriales sobre una realidad que como la del medio rural trasciende de los aspectos puramente económicos

y a la vez reforzará la coordinación para la toma de decisiones y la programación estratégica en favor del medio rural acercando su aplicación a los niveles más próximos a los problemas de la población rural y hasta aquí puedo leer

bere aldeko politika aktiboa egin beharrari buruzkoak eta lurralde orekari buruzkoak seguro que hay quien se pregunta incluso quien afirma que si el debate sigue ahí veintiuno años después es porque no se ha hecho nada y seguimos

en tanto les invito a que analicen lo que se ha hecho lo que se ha invertido lo que se ha trabajado desde las administraciones para llegar al punto en el que hoy estamos que miren

y que los miren en el dos mil diecinueve que comparen y sinceramente nos lo digan ahora bien esto significa que el asunto está arreglado no

ni en muchos años porque siempre habrá un diferencial de servicios entre zonas urbanas y rurales siempre habrá mejoras que hacer siempre habrá una tendencia centrípeta

y servicios en las ciudades grandes y siempre habrá una tendencia a abandonar el centrifuguismo

por otro lado aquella ley del noventa y ocho hoy todavía vigente ya lo dije

fue una ley muy avanzada para su tiempo fue una ley que partió

de aprobar la ley de un pacto social para el desarrollo del espacio rural vasco y que concibió un texto

entre administraciones y dentro de cada administración al lograr que toda legislación fuera informada por el órgano

para corregirla en función de la visión rural de las mismas

esa visión rural consiste tanto en la visión de estructuración territorial como en su misión de justicia territorial aspectos que son la verdadera clave de bóveda

poco a poco fue decayendo no envejeciendo que hoy está todavía vigente pero decayó para convertir esa ilusión de la visión trasversal

que no frenara las capacidades legislativas de cada departamento o de cada institución lo que evidentemente nos obliga a una nueva reflexión sobre cómo articularla sé que el gobierno ya ha iniciado su tramitación interna ya se ha dicho aquí y esperamos que acelere

y la podamos actualizar de nuevo de un modo consensuado por eso apoyamos la moción porque entendemos que es razonable y va buscando eso

bizirauteko ere como ejemplo un ejemplo ha costado mucho tiempo y esfuerzo ir convenciendo a la sociedad de que hay que abordar el medio ambiente como algo imprescindible

incluso todavía hoy hay mucho que hacer no tenemos más que mirar a estados unidos pero realmente se ha avanzado mucho en la conciencia social ha permitido también y permite que la administración en todos sus ámbitos y departamentos asuma la política ambiental como una política a considerar dentro de las políticas sectoriales

siempre va a haber una unidad administrativa que informa transversalmente lo que se está haciendo lo que se está pretendiendo hacer desde el punto de vista medioambiental y de sostenibilidad

de incrementar la sensibilización social al respecto que todo el mundo

asuman que el equilibrio territorial y por tanto el necesario desarrollo rural son imprescindibles para la continuidad sostenible de todos pero no un medio rural idílico

no un medio rural como reserva de lo que una vez fuimos para generar parques temáticos que visitar los fines de semana hace falta un medio rural vivo

con vida propia con servicios ese es el medio rural que equilibra el territorio el resto es un medio rural pasivo ocupador del territorio sí pero una reserva hecha por urbanos para el deleite de urbanos adaptar la ley es necesario hacer una buena ley es lo imprescindible pero nada servirá para lo que se pretende sin una sensibilización por parte de todas y todos de la necesidad de un mundo rural activo vivo estructurador del territorio

nada servirá en el fondo con pequeños ajustes la ley del mil novecientos noventa y ocho podía ser la llama que se necesita pero para que esa llama prenda

no es otro que nos la creamos la del noventa y ocho empezó así pero en poco tiempo

hagamos lo posible para que esto no vuelva a ocurrir y que esta moción misma la aprobemos creyéndonosla de verdad

o por mi experiencia en toda esta temática pero en definitiva si no nos lo creemos cada una y cada uno de nosotros más allá de palabras y frases concretas correctas si no logramos que el mundo urbano infinitamente mayor y más poderoso

hay que poner en marcha la justicia rural por mucha ley preciosa que hagamos poco conseguiremos más allá de acallar nuestras conciencias individuales y colectivas

mira profundamente la naturaleza y entonces comprenderás mejor que no es mirar superficialmente y no es mirar un jardín en medio de la ciudad que en general es lo que hacemos es mirar profundamente con reflexión y con corazón y es mirar en la naturaleza que es por si no lo sabían lo que está en el campo

bertatik lópez de ocariz anderea zurea da hitza sí gracias señora presidenta si me

efectivamente qué hubiera pasado si no hubiera habido ley qué hubiera pasado hubiera planes de desarrollo rural qué hubiera pasado si no hubiera

aquello que hablábamos del coste de la no agricultura yo creo que es incalculable para mí

vamos a trabajar a mí me encanta hablar de desarrollo rural de cohesión rural es lo que más me gusta lo siento pero es lo que más me gusta

me refiero a por qué tenemos el anteproyecto encima de la mesa

quince días antes de que el gobierno nos transmita aquello que le pedimos en la iniciativa

no por otra cosa por lo tanto

y que podamos trabajar e incorporar todo aquello que yo creo que en estos años desde distintos ámbitos hemos visto donde ha fallado y desde luego

taxativamente trabajar de abajo hacia arriba y eso

ni a lo que la directiva exige y yo creo que esta ocasión va a ser importante para que podamos introducir todos esos aspectos que hemos visto que no nos han aportado mucho en este periodo y como ya lo hemos visto pues creo que lo podemos mejorar y yo confió en que lo mejoremos muchas gracias

el gobierno vasco tiene múltiples instrumentos financieros tiene fondos de capital riesgo tiene créditos participativos programas para dar créditos participativos que

ayudar también a empresas que se quieren desarrollar o incluso como se está diciendo últimamente con el fondo de doscientos cincuenta millónes reiteradamente anunciado fondos y ayudas para propiciar el arraigo de las empresas pero creemos que los objetivos los únicos objetivos de los fondos

no se puede limitar a ese apoyo tiene que permitir

y tiene que permitir también que se aseguren unos derechos de participación

que están recogidos en el estatuto de los trabajadores en concreto en el artículo sesenta y cuatro

si realmente es necesario traer una iniciativa a este parlamento en relación con esa cuestión y nuestro grupo considera que sí

dos ejemplos sucedidos en esta misma legislatura el primero es el de la empresa muebles xey

que en verano del dos mil diecisiete despidió a ciento setenta personas

de acreedores con treinta millónes de euros de deuda un concurso que

apenas año y medio después ha sido declarado concurso culpable por el juzgado de lo mercantil número uno

que en su sentencia ha declarado que la dirección de la empresa acometió irregularidades contables relevantes

inexactitudes documentales graves tanto en la cifra de derechos de cobro

hacia una serie de sociedades vinculadas a los gestores de la concursada y actos jurídicos dirigidos a simular una situación patrimonial ficticia en esta empresa el gobierno vasco tenía metidos dos coma dos millónes de euros tenía el treinta por ciento del accionariado

ni detectó las irregularidades ni denunció las irregularidades ni hizo el seguimiento de las actividades de la empresa el segundo ejemplo que voy a poner es el del grupo papelero cel

un grupo que en dos mil dieciséis había tenido un resultado de uno coma dos millónes de euros en positivo y que sin embargo a principios del dos mil diecisiete dejó de pagar la luz y las materias primas

entró en concurso de acreedores con doscientos cincuenta empleos directos puestos en solfa bien el gobierno vasco tenía

y cuando están con la luz cortada cuando no están pagando las materias primas el gobierno vasco el dieciocho de mayo del dos mil diecisiete vende sus participaciones de esta empresa lo hace además

la plantilla se entera dos semanas después de esa reunión por los medios de comunicación

las participaciones accionariales las participaciones en las empresas cuando las hace una institución

quien sea tiene la condición de patrimonio público y por lo tanto están sujetos a una buena gestión pública

pública de ese patrimonio implica en primer lugar preocuparse en cómo va la empresa y en cómo van sus cuentas cómo van sus resultados y su estrategia de negociación

ojo lo digo por si acaso en segundo lugar en contribuir en que hay una menor conflictividad laboral

que hay una información y participación de las plantillas en tercer lugar a desarrollar nuevos modelos de gestión empresarial

por unanimidad y en cuya exposición de motivos de esa pnl se decía que el modelo inclusivo participativo

y eso exige el compromiso de los máximos dirigentes de la empresa y aquí tendremos que incluir al gobierno vasco cuando sea parte del accionariado decía el modelo inclusivo participativo que para implementación

se necesitará concitar las adhesiones de las personas que forman parte de la empresa y el interés de los sindicatos aprovechando al máximo las competencias de información y consulta que se atribuyen a los comités de empresa en el artículo sesenta y cuatro del estatuto de los trabajadores

contribuir a una mejor conflictividad laboral y tratar de desarrollar nuevos modelos modernos de gestión empresarial pero también

cuando la empresa entra en dificultades al contrario mantener la inversión para mostrar el apoyo público el apoyo de las instituciones a las empresas que van peor

hauei eta beno en principio nuestra disposición seguir trabajando en este sentido con independencia de lo que salga hoy porque el objeto de elkarrekin podemos no es solamente que el gobierno tome parte en las empresas eso lo hemos dejado claro desde el principio con coherencia y con insistencia diría yo sino que también el gobierno vasco

porque dar capital al capital por sí mismo no es condición suficiente para el éxito de las empresas y sí el involucrarse sí el trabajar codo a codo con las plantillas especialmente en aquellas empresas que se encuentran en dificultades

ahora que se ha puesto un poco de moda la nostalgia entre los cuarentañeros

que dice que yo fui a egb yo fui a egb y como casi todos los que fuimos a egb

veíamos un programa que se llamaba la bola de cristal y dentro de la bola de cristal había un apartado en el que solían poner

de cine más o menos de aventuras de ciencia ficción recuerdo una de esas películas se titulaba el increíble hombre menguante y cuenta la historia de una persona

su cuerpo empieza a decrecer y cada día era más pequeño y más pequeño y más pequeño hasta el punto que incluso su propio gato en casa suponía

muy pequeñita el increíble hombre menguante es el título que me ha venido a la cabeza cuando he escuchado

disposiciones del gobierno en relación a su fondo de inversión al fondo de inversión de doscientos cincuenta millónes para garantizar el arraigo en el cual

esto sí que es un fondo menguante es el increíble fondo menguante

de que el fondo vaya perdiendo tamaño de que el fondo sea cada vez más pequeño está cambiando también en términos cualitativos hay una

que consiste en poner dos fotos en apariencia parecidas pero con diferencias importantes y decir en la primera cuando lo pides en aliexpress y la segunda cuando te llega a casa

aliexpress es una especie de amazon lowcost y generalmente por lo visto porque no soy usuario suele dar este tipo de sorpresas

pues nos referimos más o menos a esto desde lejos no lo van a ver verán dos personas en elegante uniforme de marinero desde cerca veo que uno es richard gere en oficial y caballero y el otro es paquirrín en no sé qué sarao

el paquirrín y cuando veo yo que el gobierno vasco habla de un fondo de arraigo de doscientos cincuenta millónes que rinde cuentas sobre la evolución de ese supuesto fondo

fundamentales y lo considera un compromiso y luego veo las declaraciones del señor azpiazu en las que dice que van a invertir diez millónes en ese fondo pues digo hombre cuando lo pides por aliexpress y cuando te llega a casa y yo creo que esto

pero me parece bastante serio me parece bastante serio que hayamos encargado un bolso

y nos estén trayendo a casa un bolso de dolcebanana y eso

no puede ser no estamos dispuestos a que nos den este cambiazo íbamos a tener un fondo de hasta doscientos cincuenta millónes para garantizar el arraigo

que va a haber un fondo privado de gestión privada en el cual el gobierno va a invertir

si me han visto ustedes esta mañana en el parking a primera hora con el cuerpo fuera del coche y la cabeza metida dentro es que he estado escuchando a azpiazu que le estaban entrevistando y estaba diciendo no vaya a ser que dé alguna novedad y del domingo aquí haya cambiado

de la entrevista a riesgo de llegar tarde pero parece ser que no que estamos donde estábamos el domingo diez millónes de euros invertidos en el fondo y es verdad que luego se habla

a través de otros instrumentos y se habla de hasta cincuenta millónes a través del instituto vasco de finanzas pero esto supone que aquel leitmotiv de la legislatura de fondo de arraigo de doscientos millónes se ha cambiado por completo se ha cambiado por arte de birlibirloque

absolutamente a nadie y por tanto y en el mejor de los casos y suponiendo que sean diez millónes en el fondo privado de arraigo con diez millónes de inversión pública muy minoritaria y que sean cincuenta en el instituto vasco de finanzas nos encontraríamos aquello que decían los clásicos de

en castellano el parto de los montes toda una legislatura de propaganda sobre el fondo de inversión se nos queda en absolutamente en nada

aquello que empieza más o menos diciendo que cuando se despertó gregorio samsa por la mañana se descubrió convertido en un monstruoso insecto dijo ostras esto se puede hacer pero de esto se puede hacer literatura y a partir de esa reflexión de esto se puede hacer nació

y yo pregunto esto se puede hacer en política pues al parecer se puede hacer pero yo diría que no se debería haber hecho y no se debería hacer guk

en el año dos mil quince la cartera de participadas de kutxabank era de dos mil novecientos millónes en dos mil quince y no me remonto más atrás porque todavía anteriormente era mayor en dos mil dieciséis

doscientos millónes menos en dos mil diecisiete dos mil cien otros seiscientos millónes menos suma y sigue y además en una de estas memorias en las que se da cuenta de las desinversiones se menciona la de dos mil quince concretamente una de las actuaciones más destacadas del dos mil quince ha estado muy vinculada

a bolsa de euskaltel en la que kutxabank ha jugado un papel muy relevante manteniéndose como principal accionista de la compañía todavía lo vendían como una victoria luego hemos visto

hitzak propioak dira para garantizar el arraigo doscientos cincuenta millónes si te he visto no me acuerdo guk ikusi genuenean

al señor becerra y al señor casanova

creo porque señor becerra usted nos dice que hoy discutimos dónde se pone el dinero y para qué y su iniciativa decía

a garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo cuarenta y seis del estatuto de los trabajadores hasta donde yo sé ese artículo no dice para nada dónde se pone el dinero y para qué

es el derecho que tienen los sindicatos a tener información de las empresas y usted me decía es necesario traer esto lo que usted traía

pues yo consideraba que no porque si en alguna empresa se incumple

según el estatuto de los trabajadores le corresponde recibir por eso yo pensaba que no era necesaria la iniciativa que usted nos ha traído pero claro

que usted nos plantea pero dice y además voy a poner ejemplos de por qué es necesario traerlo y va y me pone el ejemplo de una empresa

a los trabajadores a los accionistas a los representantes del gobierno vasco que no se han enterado de nada y entonces le insta a ver cuando hay un filibustero en algún sitio o alguien que hace trampas en algún sitio usted eso no lo garantiza

según usted nos ha explicado hoy aquí en una de esas empresas

y hay una novedad en la transacción que usted firma porque dice y que no se vendan las participaciones y se implique en la búsqueda de soluciones cuando la empresa va mal oiga incluso aunque le hayan engañado porque como usted bien dice

en empresas es patrimonio de todos los vascos y la primera obligación del gobierno vasco es velar por ese patrimonio

no perderlo y menos que se lo roben

en esta enmienda transaccional que ustedes han planteado

o qué o el gobierno vasco yo desde luego no le autorizo al gobierno vasco a que ni el dinero de mis impuestos

en una empresa inviable y menos para que se beneficien unos malos administradores o fraudulentos según usted nos ha dicho y luego que más quiere que le diga a ver el fondo el fondo no estaba ni siquiera en la iniciativa

a ver señor casanova el arraigo el fondo

pero si sigo su argumento lo que tiene que hacer es quitar diez millónes porque en caf que teóricamente era el inicio y había puesto veinte si solo va a poner diez le sobran diez

estaríamos en esa situación y no creo que sea ese el planteamiento

lo aprobamos la semana pasada y se supone que va a venir en el mes de julio si viene mal

si no se ha aprueba pero claro yo también lo dije la semana pasada nosotros nunca hemos defendido un fondo para mantener empresas no competitivas y que no funcionan y usted señor becerra ha dicho también que estaba de acuerdo en que no había que mantenerse en empresas no competitivas y que no funcionan

y son todas claro ese es un pequeño problema cuando la excepción es la generalidad

en algún caso porque el beneficio se puede revertir de otra forma

es evidente es evidente que el fondo que todos apoyamos desde el principio va lento va muy lento no sé si va a tener las expectativas que tenía

con lo cual pues es evidente que si queremos que sea público privado y que los privados participen pues los privados sí que no van a participar para perder dinero vamos digo yo

a perder su dinero para mantener determinadas empresas aunque no sean muy rentables y yo por eso en fin como no consideraba

el artículo sesenta y cuatro del estatuto de los trabajadores lo que tenía que hacer el comité de empresa era denunciarlo directamente decirle al gobierno que cumpla la ley que no es el gobierno porque estaban ustedes hablando de los representantes del gobierno en esas empresas es la empresa la que tiene esa obligación de hacerlo y si no lo hacen los sindicatos tienen la responsabilidad de denunciarlo

pero esto se ha transformado en otro debate creo que como no daba mucho de sí la iniciativa inicial

usted no nos ha traído dónde se pone el dinero y para qué yo ya le digo para qué y dónde rentables solo rentables si no son rentables

hoy teníamos que ver o debatir una iniciativa de elkarrekin podemos que fue presentada en octubre del año dos mil diecisiete es decir que no fue ayer

de los programas de gobierno que los instrumentos que tenía para la financiación pública y el señor becerra achacaba al gobierno una absoluta opacidad en la gestión de esos instrumentos financieros falta de información gestionaba mal

y hete aquí que hoy estamos pidiendo que esa mala gestión

sirva de defensa de los comités de

una información una mejor consulta por parte de los empresarios en aquellas empresas en las que el gobierno tenga participación

pero como algo que vaya a ser novedoso o que podamos con nuestra acción en la votación del día de hoy en esta cámara francamente yo no le acabo de ver el sentido y decía el señor casanova

y bildu que planteó una enmienda también en aquel octubre de dos mil diecisiete que nada tiene que ver aquella enmienda

no nos tomen ustedes tampoco por muy ingenuos que nos hemos dado cuenta

para dar una vuelta y volver a hablar del tema de los instrumentos financieros del gobierno vasco y decía el señor casanova

de la aplicación o garantía que tiene que dar el gobierno de la aplicación del artículo sesenta y cuatro del estatuto de los trabajadores y el señor casanova que tiene por costumbre tenernos entretenidos en el inicio de sus intervenciones pues en fin darle un poco de dinamismo a esto sobre todo por las horas

tengamos un bajón de azúcar pues claro volvemos otra vez a reiterar el tema que llevamos si la memoria no me falla

y miren han llegado ustedes a una propuesta transaccional

simplemente viene a ser la antología de la participación del gobierno vasco en las empresas vascas

porque el primer punto que es el que tiene que ver con el tema del artículo sesenta y cuatro como le decía es que no podemos

que el gobierno per se ya garantiza en cualquier acción

cómo vamos a decir que el gobierno vasco se salta la ley que el gobierno vasco no cumple ese estatuto de los trabajadores que el gobierno vasco no cumple las normativas las propias las autonómicas las estatales las internacionales

en qué debate estamos el segundo punto de su enmienda transaccional se lo digo yo porque habla del modelo inclusivo participativo

hemos hablado de esto el doce de septiembre de dos mil diecisiete el veintisiete

y la última parte de este segundo punto lo hemos tratado cuando hablamos de las empresas que tenían dificultades y la intervención del gobierno vasco también tiene

el punto tercero de su enmienda transaccional pues está acordado el veintidós de febrero de dos mil dieciocho y el seis de junio de dos mil diecinueve

lo hemos aprobado en esta cámara el quince de noviembre de dos mil diecisiete vamos a ver si se trata de hacer compilaciones

pues vale pulpo como animal de compañía si lo que pretenden es ponernos en el brete de ahora ver qué van a votar cuando en su día lograron este acuerdo pues no no

porque forman parte de los acuerdos que ha adoptado esta cámara a lo largo de esta legislatura

nadie ha decidido que han perdido vigencia nadie porque no hemos elevado ningún acuerdo en contra por lo tanto no hagan trampas

digan que hoy necesitaban una iniciativa señor becerra nos ha traído una de elkarrekin podemos del año diecisiete y a ver si

igual actualizamos el asunto y no tiene nada que ver ni su iniciativa ni la enmienda que tenía bildu en el año dos mil diecisiete con la transacción

acuerdos y resoluciones de esta cámara para cada uno de los puntos por lo tanto creo que el debate ha sido de verdad bastante ficticio

que refresque la memoria es lo bueno que tienen estas cosas y te vas hasta el año diecisiete y hombre pues mira tenemos acuerdos y vas refrescando está bien para eso para eso puede servir pero eso me lo pueden decir ustedes saliendo de esta cámara

tenemos el mismo efecto yo creo que lo importante

es que hemos logrado consensuar por qué y para qué de un fondo público privado y ese porqué y para qué y las condiciones que tiene que tener ese fondo

aprobadas por una mayoría suficiente en esta cámara

es para empresas tractoras para empresas estratégicas en euskadi

dejemos ya de marear la perdiz yo se lo ruego porque es que es un esfuerzo bastante vano bastante inútil porque ni su iniciativa señor becerra

porque la enmienda de bildu del año diecisiete tampoco proponía ningún avance y porque la enmienda a la que han llegado ustedes a la transacción a la que han llegado no propone ningún avance ya están aprobados esos puntos menos el primero el tema del artículo sesenta y cuatro del estatuto de los trabajadores que no viene al caso

debe si no que respeta tiene que respetar todas las normativas vigentes nada más eskerrik asko

peculiar peculiar iniciativa tan peculiar que no sé lo vimos y ni presentamos enmienda nosotros que solemos habitualmente presentar enmienda

esta iniciativa pero ya vemos que no si esta proposición no de ley señor

hubiera sido un buen vino hoy sería ya un reserva

hoy es una iniciativa mucho peor de lo que era hace dos años solo tiene olor a madera la madera del cajón de su mesa o no

trampa la utilización del engaño volver a traer aquellas cosas que ya estaban tratadas volver a traer aquellas cosas como ha dicho la señora corcuera sobre las que ya hay acuerdo

segundo tercero y cuarto del texto transaccional que ya que ustedes han acordado

al señor tellería que iba a salir aquí como un duerman seguramente yo creo que también tiene ese objetivo

la única novedad que tiene lo que usted nos planteaba y lo que nos siguen planteando en el punto primero es eso es el punto primero del actual texto que son los dos puntos de su iniciativa original

a mí no me va a despistar señor casanova

su justificación no me olvido de su justificación en su día su justificación decía

de industrialización diecisiete veinte utiliza diferentes instrumentos financieros de acuerdo de todos los instrumentos a usted le interesan unos más que otros

me da esa sensación y así más o menos lo dice por qué le interesan tanto esos instrumentos porque implican la entrada en el accionariado de las empresas incluso dice usted pueden implicar a los consejos de la administración bien

pero a usted a esto le ve un pero

temporal esto en la práctica significa que se tiene poco peso en el accionariado

en el órgano de representación cuando se llega a los consejos de administración y este poco peso implica

no se puede condicionar las decisiones estratégicas y usted hoy se viene se aplaca un poquitín llega a esta tribuna y dice

usted dice condicionar las decisiones estratégicas usted dice controlar usted dice intervenir intervenir en esas entidades cuando yo leo

no leo eso leo apoyar leo apuntalarle impulsar potenciar fomentar desarrollar reforzar

están consiguiendo más industria que la industria se vaya acercando al veinticinco por ciento del pib de la económica vasca están consiguiendo mejor industria

conexión entre necesidades empresariales y disponibilidad de perfiles profesionales y están

todo ello nos está ayudando a conseguir los objetivos relacionados con el bienestar de la ciudadanía vasca más empleo más riqueza

el gobierno vasco avanzando en sus objetivos y usted dos años metido en su cajón en su cajón de madera con su iniciativa gran reserva

más de su justificación bueno pues como no pueden controlar estos señores los que representan a esos consejos de la administración a la administración general

equivocadas porque parece que las decisiones de las empresas vascas siempre son equivocadas y nos cotilleen las malvadas intenciones de los consejos de administración y da un salto más

que es el tema de hoy y esta afirmación que usted escribe es muy grave usted puede

el gobierno vasco puede tener y tiene preferencia por otras también lícito yo puedo pensar y pienso menos mal que gobiernan estas señoras y señores

y también es lícito pero lo que no es lícito lo que no es lícito es faltar a la verdad y cuando usted dice no no

usted está dando por hecho que no se cumplen con carácter general las obligaciones que establece el artículo sesenta y cuatro del estatuto de los trabajadores y eso es faltar a la verdad

nos sometía a un texto a consideración hoy nos somete otro hoy somete otro

las dos partes que antes estaban separadas en la primera de estas partes instaba al gobierno a garantizar el cumplimiento del artículo sesenta y cuatro del estatuto de los trabajadores una cuestión previa el cumplimiento de las obligaciones contempladas en ese artículo

que en una empresa pueda tener el gobierno vasco es de obligado cumplimiento cuando leí por primera vez esta iniciativa fui rápido

es una mala costumbre lo reconozco y pensé igual podríamos plantear un que siga garantizando el cumplimiento

cumple con esas obligaciones en el ámbito de su competencia pero al ver el falso escenario el falso escenario que usted marca en su justificación

considero que tiene algunas regulaciones confusas insuficientes y ambiguas muchas de ellas pero siendo la regulación con la que hoy tenemos que trabajar y potenciando lo que en ella hay de positivo creo que se puede incrementar la importancia

y creo firmemente que no hay que limitarse a la negociación del convenio sino que hay que trabajar día a día en la aplicación y en la mejora de lo negociado y en ese día a día

que es el auténtico tema de hoy el impacto

por la que se establece el marco general europeo relativo a la información y a la consulta a los trabajadores y trabajadoras parte de la consideración

ejercitados con la suficiente antelación constituyen una condición previa para el éxito de la adaptación de las empresas a las nuevas condiciones a las que se tienen que ir enfrentando entendidos así los derechos de información y consulta son la herramienta básica de una acción sindical participativa y con el planteamiento que usted

sus competencias en esta materia es gravísimo señor becerra se carga toda la regulación

no el artículo sesenta y cuatro todo el título segundo la parte segunda de la primera parte de hoy

en el punto segundo del texto que sometía

vías de interlocución directa entre los representantes de la administración vasca en el consejo de la empresa y la representación legal de los trabajadores y trabajadoras en la misma aquí hablamos del deber de secreto de los administradores y el artículo

los datos los informes los antecedentes es inherente al desempeño de su cargo de los administradores incluso cuando hayan pensado en él y dice ese mismo artículo salvo en los casos en los que la ley lo permita

el sesenta y cuatro al que usted hace referencia es uno de esos casos es uno de esos casos es decir y atendiendo a lo que dice

ese deber de secreto se amplía al comité se puede ampliar al comité

esta cuestión en la ley de sociedades anónimas la del mercado de valores yo sacaría una conclusión

todos los administradores son sujetos obligados por el deber de secreto

siendo irrelevante la estructura del órgano de administración cuando usted escribe que el gobierno vasco establezca vías de interlocución directa

y la representación de la plantilla a mí me gustaría conocer qué materialización tiene ese concepto su concepto de vía de intermediación de interlocución directa a qué se refiere a que puedan hablar o se refiere

por ese representante en este caso de la administración vasca en el consejo de administración

a fin de que este el comité tenga conocimiento de una cuestión determinada y pueda proceder a su examen acláremelo acláremelo

es del empresario dice el estatuto de los trabajadores y ya le anticipo que no es materia delegable no juegue al despiste

en cualquier caso me gustaría que también me respondiese a esta pregunta si hay un incumplimiento tan flagrante y tan generalizado y con tanta relevancia

por qué ha esperado dos años eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos

algunos grupos en las intervenciones de los demás pero es cierto que cada vez

debates en los que no tienen argumentos y por lo tanto derivan por otro lado ustedes ven gravísimo que nosotros planteemos

en el que no se ha cumplido sin embargo no ven grave que esas decisiones

es gravísimo incumplir la ley pero no es gravísimo que se quede un montón de gente en la calle precisamente por no haber hecho el gobierno en su momento los deberes yo he dicho por escrito en nuestra propuesta

minoritarias y temporales y por lo tanto no es administrador

del deber de secreto es para quien administra la empresa cuando el gobierno vasco decide vender

y tiene una reunión con la plantilla y no se lo comunica no está incumpliendo ninguna obligación de secreto ninguna ninguna

simplemente pasa de la plantilla pasa de la plantilla pasa de la plantilla yo efectivamente señor yo no quiero que el gobierno pierda su patrimonio al contrario quiero que el gobierno gestione bien su patrimonio existen múltiples procedimientos de reintegro patrimonial cuando el gobierno entiende que su dinero ha sido mal utilizado tampoco en eso es diligente el gobierno en alfa lan metió un montón de millónes

el equipo directivo se repartió según recibió el dinero con una mano se repartió dos coma cinco millónes de euros y el gobierno nunca pidió cuentas sobre eso

ahí podríamos encontrarnos pero el gobierno se dedica a dar el dinero y luego no hace nada más

precisamente porque al poco de presentarla nosotros el gobierno anunció su fondo de doscientos cincuenta millónes de euros y dijimos no vamos a condicionar el primer debate

formar un fondo con el que estábamos de acuerdo no vamos a condicionar el debate de dónde se mete ese dinero vamos a esperar a que llegue ese fondo

porque efectivamente el gobierno sigue sin presentar su fondo es cierto que el lehendakari ha anunciado el pasado diez de junio

activará el fondo para entrar en grupos estratégicos y el señor lehendakari textualmente según las noticias de prensa ha dicho contamos ya con los estudios previos que nos van a permitir tomar participaciones en empresas vascas pues bueno ese mismo día que el señor lehendakari hacía esa declaración se publicaba

la contratación de un estudio a la empresa analistas financieros internacionales con un plazo de seis meses de entrega seis meses es decir se entrega

sobre un fondo de arraigo económico en el país vasco les suena es la quinta vez ya que se presenta que se anuncia la creación de un fondo

y en la plataforma de contratación del gobierno vasco todavía no se han contratado todavía no se han recibido los informes jurídicos que necesitan para ponerlo en marcha

se está engañando a la gente una vez más otra vez más cómo puede decir señora corcuera

que se están respetando los acuerdos en el acuerdo que ustedes firmaron con el señor casanova y yo entiendo perfectamente el cabreo que pueda tener el señor casanova porque nosotros ya dijimos que no suscribíamos ese acuerdo

y veo que hicimos bien el segundo punto el segundo punto al cual condicionamos toda nuestra atención decía el parlamento vasco

en el marco del primer semestre de este año de este año del dos mil dieciocho dónde está el fondo

nada me parece muy bien que tengan un cabreo excepcional ante nuestra propuesta no tengo nada que decir a eso pero a mí lo que me parece es que la falta la ausencia de política industrial de este gobierno es clamorosa

es grave pero a mí lo que sí me parece es que el grupo popular que hasta ahora ha demostrado bastante más sentido común no debería seguir siendo cómplice de todo esto porque en un año y medio hemos tenido la naval

y sigo y sigo y sigo y no hacemos nada en este país eskerrik asko becerra jauna

debería comenzar celebrando que la iniciativa vaya a ser aprobada a tenor de lo escuchado a la señora corcuera porque ha repasado todos los puntos de uno en uno y está de acuerdo ya está aprobado con sus votos pues me imagino que repetirá la votación

que se vota reiteradamente en la misma dirección no estarían rompiendo

voten a favor y la iniciativa por lo menos ya tiene mayoría para salir adelante es verdad que ha habido una

esta moción también esta proposición no de ley ha cambiado desde su redacción original hasta la transaccional

hice las enmiendas correspondientes en los plazos

pero es verdad que ahora existía la oportunidad de llegar a una transacción y de actualizar contenidos y sin renunciar al contenido original actualizar contenidos y ponerlos en conexión con

de urgente actualidad y que tienen relación efectivamente con el núcleo de la moción que era cómo invierte el gobierno vasco y cómo gestiona sus inversiones desde esa lógica se han introducido aspectos nuevos aspectos nuevos o algo fundamental yo creo que tenemos que explicar hasta lo más elemental

cómo se gestiona señor damborenea una empresa en crisis y si hay un momento en el que hay que invertir capital a una empresa en crisis eso va por un carril otra cosa es el capital riesgo y el capital que se pone al inicio de una aventura empresarial

y otra cosa es la inversión estratégica en empresas ya consolidadas

son tres cosas distintas y como estamos hablando de cosas distintas lo que necesitamos son instrumentos distintos

y ese sistema de instrumentos tiene que ser actualizado y tiene que ser armónico porque precisamente es un sistema

cuál es el sistema cuál es la propuesta de sistema de inversión en los diferentes niveles

o de fomento del arraigo de empresas estratégicas que lo haga con claridad porque cuando se habla de un fondo de doscientos cincuenta millónes para el arraigo público privado y ahora se nos está hablando de un fondo privado en gestión

se comunica con este parlamento incluso cuando usted tenía un acuerdo

no nos esteramos y ahí en donde ponía diez millónes diez millónes decía azpiazu

como dijo también el señor urkullu el capital riesgo no es invertir en euskaltel no es invertir hubiera sido en su momento en más móvil pero invertir en euskaltel no es capital riesgo

y por eso necesitamos instrumentos distintos necesitamos claridad y necesitamos rigor pero claro para ofrecer claridad a los demás primero igual tiene que tener las cosas claras uno mismo y lo que me parece es que este gobierno

y hemos llegado a una última versión del fondo que le hace irreconocible que se parece al original

pero en el fondo es absolutamente distinto y los pactos efectivamente

claro que están firmadas pero no están cumplidas es como si alguien tiene una deuda y le dice que le paga con un cheque sin fondo o le da una nota diciendo te voy a pagar

pero es que no nos los has pagado si yo llego a un acuerdo el objetivo de ese acuerdo no es estampar la firma en un papel

yo tengo el derecho y la obligación de exigirlo o en todo caso que se dé una explicación de porqué no ha sido

efectivamente está bien firmarlos pero pacta sin ser banda los acuerdos están para cumplirlos

no entiendo por qué se extraña de que venga aquí precisamente a exigirlo el acuerdo que firmamos el acuerdo que firmamos porque

el fondo que se va a presentar no es el fondo que usted acordó porque usted dijo que se presente el fondo que reiteradamente se ha idealizando desde el principio de la legislatura y ese no es el fondo que nos van a presentar es que nos lo están diciendo ya que no es que ha habido un cambio entonces claro cómo quiere que vengamos aquí pues con una sonrisa porque

al meollo de la cuestión que esto no es una peleíta entre partidos esto es un problema de fondo de este país

fallando en retos fundamentales como crea poco empleo y de mala calidad como que hay un desplome en la natalidad como que estamos yendo hacia atrás a marchas forzadas

como que los salarios son donde menos crece en la comunidad y menos crece en el estado y ahora tenemos también que

estamos a las puertas o estamos ya viviendo un problema grave de pérdida de arraigo de empresas y ante eso llevamos tres años como decía mi aita

pues ya el malo se ha escapado y no tenemos los instrumentos que deberíamos haber tenido ya hace mucho tiempo para hacer frente a este problema del arraigo y mientras tanto

poniéndonos en este tono conseguimos que haya algún tipo de reacción

real no en el periódico sino a través de algún tipo de documentación

muchas gracias señora presidenta yo no pensaba salir pero me han llamado cómplice y lo mío es más ejecutar y digo por comentar señor becerra

volviendo al inicial el ejemplo que usted nos ha puesto de cómo a los sindicatos se les ha engañado y los representantes del gobierno vasco en esa empresa no se enteraron de nada oye si no se enteraron de nada cómo le iban a explicar nada a los sindicatos

ver había gente metiendo la mano en la caja haciendo ilegalidades

su propuesta no arregla nada es más su propuesta es contraria del estatuto de los trabajadores porque el estatuto lo que dice

de comunicar a los comités de empresas no un fulano miembro del consejo

eso es otra cosa y lo sabe usted perfectamente hombre ha sido el propio señor

de transmutación de la iniciativa en el debate que estamos teniendo

lo es por lo tanto bueno pues estamos hablando no de lo que usted traía sino de lo que estamos hablando

yo no confundo capital riesgo que como su propio nombre indica riesgo

pero eso va de suyo eso va de suyo en cualquier

y si se llama capital riesgo es porque se está apostando por aportar

determinadas empresas para ver si salen y evidentemente con el tiempo

y el fondo de inversión del principio de la legislatura que no tenía nada que ver una cosa con la otra y claro señor casanova me dice y se fía usted del gobierno vasco quién yo

porque a lo mejor soy el que más acuerdos ha llegado con este gobierno vasco

a mí la semana pasada el gobierno vasco me ha aprobado la creación de este fondo tal y como se dijo en su día el próximo mes de julio yo por qué no le voy a creer de momento bueno pues es el mes que viene si me hubieran dicho

pero claro pero si me dice que es en el mes de julio pues ese margen se lo damos le llevamos dando un margen de año y medio o dos años prácticamente desde que fue el anuncio de la legislatura la creación de este fondo

lo que sí espero es que ese fondo sea realmente lo que se planteó que iba ser y que evidentemente tiene que tener una dotación suficiente y necesaria

yo lo que no estoy viendo es que el gobierno junto con las diputaciones tenían que estar planteando desde ya

van a tener en ese fondo por qué va a entrar alguien privado en ese fondo público privado

primera y por supuesto que tiene que tener beneficios y rendimientos y por supuesto que es para el arraigo de las empresas y para que nuestras empresas puedan crecer pero si el problema que tienen muchas empresas que no vienen aquí es porque entre en fin digamos que históricamente se les ha maltratado desde luego

segundo fiscalmente esto no es solvente porque depende

y nunca generalmente no suele ser a bien y tercero

le interesa estar en un sitio con cierta estabilidad institucional

eso no favorece que vengan empresas ni que se queden las que están y lo sabe usted

solo tiene que fijarse lo que pasó en cataluña no hace tanto

el efecto no es importante pero si eso nos ocurriera aquí

al día siguiente teníamos que cerrar la ventana la persiana de esta casa eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak

gracias presidenta vamos a ver señor becerra sin ningún tono burlón si lo decía por mí por si acaso
se lo quería confirmar mire usted tiene un problema y su grupo también

tiempo es que como ustedes no están de acuerdo con nada

ni con el plan de industrialización ni con el plan de emprendimiento

todo lo que tenga que ver al menos en lo que es la comisión de desarrollo económico e infraestructuras pues claro

los demonios porque claro ustedes no hacen nada

me puede decir qué ha avanzado qué hubiesemos avanzado

que el gobierno vasco garantice a través de sus participaciones en las empresas el cumplimiento del artículo sesenta y cuatro del estatuto de los trabajadores me quiere usted decir además del puro voluntarismo qué hubiesemos avanzado bueno pues que igual usted pone

en esas iniciativas que va aprobando elkarrekin podemos porque más no se me ocurre se lo digo con total sinceridad mire en el año dos mil diecisiete

el acuerdo una resolución en la que instábamos al gobierno vasco a revisar los instrumentos financieros y los programas

existentes en la actualidad en colaboración con los distintos agentes económicos y sociales para incrementar su efectividad

presente y futuro garantizando crédito a las pymes e impulsando la inversión productiva en sectores

le aprobamos alguna resolución que otra pero usted prácticamente había hecho una enmienda a la totalidad creo recordar que ustedes presentaron la enmienda a la totalidad del plan de industrialización

y usted erre que erre y sigue insistiendo pero sigue sin dar pasos

avanzamos si no avanzamos con la enmienda que han transado ustedes con bildu sigo diciéndoselo obedece a acuerdos que ya ha adoptado esta cámara

de lo que ya ha acordado esta cámara y señor casanova evidentemente no se lo voy a aprobar vamos a ver nuestra función no es estar aquí reiterando hasta la saciedad los acuerdos que ya hemos adoptado a ver si en uno nos hemos equivocado y va y cuela una de esas que ustedes quieren meter

cómo que a ver si me lo aprueba porque ya está aprobado y claro no va usted a contradecir

podría pasar pero de verdad tómenos por alguien o por gente un poquito más inteligente porque nos hemos dado cuenta ni lo que usted proponía en el año dos mil diecisiete ni lo que usted propone ahora pactado con podemos da nada digamos no avanza no procura el desarrollo de nada ni de ese fondo público privado que a usted tanto le inquieta ni absolutamente nada de nada las medidas por un modelo inclusivo participativo ya están adoptado

o cada jueves los mismos acuerdos a los que hemos llegado porque ustedes están en una especie de juego de trileros como no me sale la enmienda

y no no porque no puede funcionar así cuando no me gusta no participo en la votación claro es que estamos todo el día jugando con unas reglas de juego un poquito extrañas yo lo que sí les pediría es que

con nosotros que tuvieran en cuenta que hace

semanas no días elkarrekin podemos también hablaba de ese fondo público privado y planteaba la banca pública es que no está de acuerdo con el fondo público privado

alto y claro entonces decirles que lo que pretendían con la iniciativa

nada tiene que ver con lo de hoy que se han dado muchos pasos que en esta cámara hemos trabajado

nada que reiterar todo dicho y acordado otra cosa es

y para eso estamos convencidos de que nunca podremos contar con ustedes gracias

bueno señor casanova estamos de acuerdo en dos cosas hoy increíble

de acuerdo en que usted se transmuta la metamorfosis y esas cosas

su iniciativa y su enmienda y además me gusta y me lo voy a apuntar me gusta y me lo voy a apuntar

a la urgente actualidad lo vamos a apuntar eso es muy interesante estamos de acuerdo en que se transmutan y estamos de acuerdo estoy de acuerdo

en que esto no es una peleíta entre partidos estos son dos concepciones dos concepciones

de las relaciones laborales del derecho laboral sí si por lo que yo estoy viendo en lo que ustedes firman hoy sí pero bueno estamos de acuerdo

las formas señor becerra el cabreo y tal no sé si lo decía yo creo que no lo decía por la señora corcuera yo creo que tampoco lo puede decir por mí no estoy

pero no cabreado en ningún caso de las dos cuestiones que le planteo de las dos cuestiones

contesteme a esto no me ha aclarado ninguna de las dos y son la clave

de su iniciativa original y del punto primero que es la única novedad que va en este debate

si algún día quiere me las aclara dice también incumplir la ley el gobierno no incumple la ley el gobierno no incumple la ley

y una ley de obligado cumplimiento como esa el gobierno la está cumpliendo la está cumpliendo pasar de la plantilla esto también

me esto casi sí me enfada pasar de la plantilla

el gobierno no puede pasar de la plantilla no pasa de la plantilla y no puede pasar de la plantilla

no pasa de las empresas y las plantillas son parte de la empresa porque respeta porque este gobierno respeta a las empresas

y en la medida de sus posibilidades las impulsa las potencia las fomenta fomenta su actividad

lo que significa no pasar de la plantilla sino impulsar fomentar esas plantillas

y de la calidad en el empleo no pasa pero y usted y usted qué es lo que hace usted respecto a las empresas lo que pretende es controlar a las mismas así nos lo dice sí sí así nos lo escribe

se trasmuta como el señor un poquito se trasmuta un poquito no no ya lo he leído

ser determinantes en esas decisiones de esta manera control

usted lo que hace con la iniciativa lo que usted está haciendo es

de las plantillas de los trabajadores sí sí tutela con esa iniciativa usted tutela

de representantes de trabajadores alguna vez ha leído un manual de representantes de los trabajadores que suelen

donde se explica cómo tienen que ejercitar esos derechos y a qué obligaciones están sujetos usted les quita eso y les pone su iniciativa en cualquier caso

no hacemos nada en este país hable por usted no por este gobierno eskerrik asko aiartza jauna eztabaida amaitu dugu

bozka hogeita zortzi boto aldekoa cuarenta y cinco contra beraz